aunque hayan pasado algunos años no ha cambiado mucho la manera de proceder

desde que un parlamentario en esta cámara hoy en el gobierno entonces en la oposición acusara a los responsables del ente entonces en el gobierno

de impulsar unos servicios informativos profundamente tendenciosos y que no responden a lo que son los criterios de una radio televisión pública

creemos que a día de hoy también existen razones para alzar la voz ante unos servicios informativos profundamente tendenciosos y que no responden a lo que son los criterios de una radio televisión pública se ha olvidado aquello que da legitimidad a una función social de los medios olvido relacionado con que no necesariamente se sirve al interés informativo sino otro tipo de interés que desfigura

zeharo partziala den ariketa batetara pasatzen gara se pasa de un ejercicio informativo objetivo a la función social de un medio de comunicación público y a los tiempos que vivimos a un ejercicio parcial sesgado más propio de el gato al agua

ocurre en un noticiario en el que la presentadora se toma el gusto de hacer valoraciones de parte que lejos de aportar nada desde el punto de vista informativo pretenden crear opinión con comentarios de nulo valor informativo

intencionalidad mucha intencionalidad que están totalmente fuera de lugar en un noticiario de un medio de comunicación

la oportunidad de hacer dichos comentarios una valoración de juicio que en todo caso correspondería a los y a las telespectadoras hacerlo

los medios pueden mostrar una imagen sesgada de la sociedad y sus valores o ser el reflejo de la pluralidad que hay en ella e i te be a nuestro entender

hoy las mujeres están parando el mundo han impulsado

y una vez más desbordando las formas conocidas y tradicionales de reivindicación y de propuesta dicho hoy esta propuesta le tocaría

precisamente a esta huelga en defensa de los derechos y de las reivindicaciones de las mujeres

si vamos al punto me gustaría empezar por plantear que cuando abordamos la cuestión de los informativos de e i te be supone hablar de la función que tiene este ente como servicio público una función que se recoge tanto en la ley de e i te be como en el contrato programa y de hecho una de estas funciones de las más importantes es la de ofrecer

veracidad e imparcialidad en las informaciones algo que a día de hoy y desde hace algún tiempo no se está cumpliendo

es decir e i te be a día de hoy no cumple eficazmente con su misión de servicio público que por cierto tampoco en otras muchas cuestiones aunque hoy no las abordamos cuestiones que nos han hecho por ejemplo plantear la necesidad de la dimisión de su directora esta semana pasada es sorprendente

de la dirección de e i te be para afirmar que en cambio cumple con este compromiso

su éxito o su cumplimiento del compromiso de los criterios de objetividad veracidad e imparcialidad a través de las horas de emisión

un indicador que a nosotros nos parece curioso como se emiten miles de horas al año

según la dirección de e i te be esto es la garantía de que sus contenidos son objetivos son veraces y son imparciales y ya hemos comentado alguna vez que esto pues es una cuestión de primero de sociología medir una variable cualitativa como puede ser la imparcialidad como objetividad con indicadores cuantitativos horas de emisión es del todo insuficiente además de ridículo

realizando mediciones de sus contenidos y análisis de los mismos y las principales conclusiones que aparecen en estos informes son que son informativos con un porcentaje mayoritario de información política algo que además es extensible

en los que se mezcla opinión con información esto es las tertulias también espacios informativos que ocupan gran parte de la parrilla de e i te be de la cual la información dedicada al gobierno es absolutamente mayoritaria actividades del lehendakari declaraciones actos de departamentos presentación de planes etcétera el tratamiento favorable a todos ellos a todas ellas es evidente tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo

otro porcentaje importante de esta información se lo lleva y está dedicada al mundo de la empresa por no decir directamente a las grandes empresas con un enfoque que siempre

al incumplimiento de normativas medioambientales brillan por su ausencia el enfoque siempre es positivo

al resto de agentes políticos sindicales partidos políticos movimientos sociales pues generalmente un espacio subalterno o en muchas ocasiones ningún espacio

como es el caso de la información deportiva cuando hay que recurrir a una opinión experta

los que aparecen casi nunca mujeres qué espacio y qué tratamiento reciben las minorías mínimo y con enfoques

generalmente vinculadas a informaciones sobre delitos y sobre conflictos sociales esa es la imagen que presenta nuestra televisión pública de las minorías

estamos hablando de imparcialidad cuando hablamos de las campañas de marketing o del anuncio de planes también suelen estar ausente los espacios informativos a la sociedad civil en muchas ocasiones nos sonrojamos contemplando un publirreportaje gubernamental

de crónica informativa no hay nadie ningún agente social en el país que tenga algo que decir al respecto pues parece que en la mayor parte de las ocasiones no lo hay pero hoy desde luego no queremos

de los profesionales del ente instamos también aquí para hacer una defensa cerrada de la profesión periodística somos conscientes todos

y precisamente peculiar sistema de gestores y a través de externalizaciones no son quienes debieran hacerlo

sin presiones o sin tutelajes de ningún tipo

no cumple con los estándares en lo que respecta a la misión de servicio público en lo que se refiere a los informativos hay muchos modelos de buenas prácticas a los que se puede mirar y de los que nos podemos inspirar no es tan difícil se trata de garantizar consejos de redacción

que hagan su trabajo y que puedan hacer su trabajo eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

gracias presidenta bien como saben la responsable de mi grupo para fijar posición

es rafaela romero que como el resto de mis compañeras han decidido secundar la huelga convocada en todo el mundo en defensa de la igualdad plena de las mujeres lo hacen porque todas aquellas por todas aquellas que ni siquiera tiene el derecho a la huelga

y porque siguen siendo la parte más débil de la sociedad las parlamentarias han decidido hoy

y todas han podido tomar esa decisión con una libertad de la que por desgracia carece una parte importante de la sociedad que es lo que hoy se pretende visibilizar

quienes nos ocupemos de lo que habitualmente se ocupan ellas dentro y fuera de los hogares también en este parlamento los compañeros de mi grupo que estamos aquí respondemos a esa voluntad y nos sumamos a la misma demanda que quienes hoy no están en el parlamento

es verdad yo no llevo esta materia pero sí soy espectador yo también veo de vez en cuando etb y tengo que decir que a mí tampoco me gusta mucho lo que veo que tampoco creo que las posiciones de todo el mundo salgan bien reflejadas incluso a veces ni salen reflejadas

me puse a preparar este debate una de las noticias del día en etb fue el pacto unánime por la seguridad en bilbao y en teleberri se puso voz exactamente a todos los partidos

lo que para algunos es exceso gubernamental a nosotros nos supone que nos subsuman en los gobiernos

pero es que creo que esa propuesta informativa por desgracia no le interesa a la mayoría de la ciudadanía a pesar del liderazgo que tiene los informativos de etb están eligiendo mayoritariamente

para estar al tanto de la información lo que sí me parece sorprendente con esta iniciativa es quién la plantea y qué suele decir cuando otros apuntamos defectos

cuando en esta o en otras legislaturas se ha reprochado que por ejemplo desde programas de la casa se ha insultado a quienes se sienten españoles ustedes apelen a la profesionalidad que cuando se ha reprochado que se emita un programa que habla de os presos de eta o sus familias

por las que esas personas están en la cárcel ustedes apelen a la profesionalidad

en lugar de que gire todo sobre los problemas de los independentistas catalanes ustedes apelen a la profesionalidad y lo que es sorprendente es que hayan rescatado ustedes de su fondo de armario iniciativas como esta

un discurso exigente hacia etb porque ustedes salgan menos que el gobierno queja que no tenían por ejemplo cuando el diputado general de gipuzkoa era de su partido

es que salen ustedes y salen todos los grupos y asociaciones que apoyan exactamente las mismas tesis que ustedes que otros en ese sobreminutaje que tenemos aparecemos por razones informativas objetivas como han podido ser problemas internos pero nuestra posiciones propias nuestras iniciativas no tienen ese eco

pero eso tampoco es nuevo compañeros míos lo han dicho en otras ocasiones hace varias legislaturas los grupos de esta cámara decidimos solicitar a la dirección del ente

lo hicimos creyendo que podía ser una buena manera de medir los equilibrios y la pluralidad

inadecuada por lo que acabo de decir porque no se trata solo de los segundos que ocupas sino sobre qué se ocupa el sentido de las palabras que se hayan seleccionados los temas por lo que

pero yo creo que eh bildu lleva una trayectoria interesante de pedir informaciones

sobre cómo tratan su información no sobre cómo se garantiza la pluralidad

lo que nos lleva a deducir que les interesa más que la independencia informativa la información proindependentista que es algo muy distinto si de lo que quieres hablar es de independencia informativa

le diré más hace ahora justo tres años mi partido presentó una propuesta en este parlamento para cambiar a e i te be en toda su estructura que entonces fue desdeñada

en la ponencia y como no creemos que eso de la independencia consiste

hablamos de las cosas que están en el fondo como el desarrollo de la carrera profesional para que sea una realidad que garantice una línea continua de independencia desde el ámbito directivo o gestor

la independencia y la pluralidad y eso es lo que venimos a defender hoy

para la reforma integral que lo haga posible y una valoración de cómo percibe la ciudadanía esa pluralidad a través del sociómetro que creo que es algo en lo que está la ponencia ahí estaría bien preguntar a la ciudadanía si percibe a la televisión más cercana al nacionalismo si la ve plenamente independiente o si ustedes quieren les parece que es demasiado españolista

mientras acaba esa reforma como socialista y como espectador espero que en los espacios de la casa tengamos ocasión no solo de sumar minutos de unos y otros

y valoraciones no por nosotros por quienes salimos en la tele sino por los que creemos que ven la tele por la ciudadanía que es plural y necesita razones para reconocerse
de verdad y plenamente en nuestra radio televisión pública eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

objektibitatea frogatzen duten datuak nos parece un poco

hablando y acusando a e i te be de unas presuntas faltas de objetividad informativa cuando no se aportan ningún dato cuando esta opinión cualitativa no tiene detrás unos datos cuantitativos que pueden decir si sí o si no el señor urruzuno nos ha dado una clase de teoría general de la información que se le agradecemos muy subjetiva y simplemente

ha puesto dos ejemplos dos casos que e i te be ha reconocido como error pero habida cuenta que es la emisión son más de cien horas diarias

de error bastante aceptable y nos parece grave por una sencilla razón porque cuando hablamos de la falta de objetividad de e i te be no estamos hablando de la falta de objetividad

en teoría de la falta de objetividad de los más de trescientos periodistas y redactores que conforman la redacción de e i te be de radio euskadi de eusko irratia

y nos parece una acusación bastante bastante fuerte también por consecuencia estamos hablando

que e i te be tiene una información que no es objetiva y tenemos que reconocer que los oyentes y los televidentes de los informativos del grupo e i te be son líderes en los informativos pues evidentemente

los redactores no son objetivos los espectadores tragan con todo lo que le echan algo hay mal y lo que hay mal es que en sus dos propuestas

materializaban esa opinión con cifras que es lo que traigo yo hoy aquí la

y que está ahí en una nube y la objetividad es una cosa que todo el mundo aspira a obtenerla

integral y objetiva yo tengo otros grupos de datos para intentar convencerles de que lo que nos han propuesto no tiene ningún tipo de sentido y no cumple mucho con la veracidad el primer dato

señor martínez hay un consejo de redacción hay un estatuto de redacción que lleva funcionando mucho tiempo y yo simplemente le voy a leer

no es el dedo índice de la directora general que se posa en la cabeza de una persona no es eso pasa evidentemente por una criba de redacción artículo cincuenta y siete

artículo sesenta y cinco la dirección comunicará confidencialmente a sus respectivos consejos de redacción

artículo sesenta y seis el consejo de redacción los periodista del ente público

y por último todos los nombramientos de directores jefes editores de los medios de e i te be han cumplido los requisitos de consulta al consejo de redacción sin que haya existido nunca

los que responden de la información en e i te be no son nombramiento directo de la dirección son los propios periodistas del ente insisto más de trescientos reunidos en consejo de redacción quienes tienen el derecho de veto quienes pueden decir este sí este no y hasta ahora

de la dirección han sido aceptadas y bienvenidas por el consejo de redacción y la dirección a su vez evidentemente ha nombrado

no podemos hablar señor martínez del consejo de redacción cuando sabemos que existe para qué vamos a nombrar otro

que los interesados que son los profesionales de la comunicación de e i te be están

segunda batería de datos para probar que ustedes han hablado con mucha subjetividad hoy y con poco

objetividad los datos de audiencia e i te be tiene que pelear todos los días contra grupos

y como puede ser en radio pues cadenas con una implantación y con un presupuesto evidentemente que multiplican con varios ceros el de radio euskadi y el de eusko irratia y sin embargo en el estudio general de medios el año pasado

personas con una cuota de mercado del veinte coma cinco por ciento es decir la quinta parte de la audiencia en euskadi de informativos lo veía a través de e i te be la radio

tenían en su momento de información de madrugada de seis a

doscientos diecinueve mil oyentes con una cuota de mercado del treinta y ocho coma seis por ciento

entraban en internet para temas informativos eran dos millónes ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cuatro

esta cifra ha subido a dos millónes trescientos veintitrés mil doscientos ochenta personas

si tantos oyentes y tantos vascos de cualquier pelaje político a la hora de informarse quieren escuchar las radios de e i te be y quieren ver e i te be por algo será es decir yo si todo el mundo pensara como ustedes dos de que la información no es nada objetiva pues evidentemente optarían por otro tipo de

la tesis nuestra de que evidentemente la información en e i te be es objetiva y que no se le puede acusar con tanta

de falta de objetividad a los informativos de nuestra televisión pública vasca

somera es como ustedes sabrán todos los meses e i te be al parlamento vasco una detallada lista del minutaje

el partido socialista yo creo que sale casi casi a la par más o menos por elkarrekin podemos también sale quizás a la par pero oh sorpresa creo que bildu decía algo así como que acusaba a e i te be de tratar muy bien no solo al gobierno vasco sino al partido

informes del año pasado pero aquí tengo tres a boleo enero junio y diciembre del diecisiete y lo que se ve es todo lo contrario que ustedes dicen es decir aquí hay una comparación de

de voto tiene y luego qué cuota qué porcentaje de tiempo en antena tiene un poquito para ver si hay proporcionalidad entre la representación política y lo que e i te be les concede

en e i te be en informativos la media no llega al quince es decir que

de lo que en teoría podría corresponderle elkarrekin podemos casi sale a la par meses sí meses no el psoe también lo hemos dicho y el pp dobla también es decir el pp tiene una representación en votos del diez coma dieciocho por ciento y sin embargo la media les sale

el doble de tiempo que en teoría merecería por su número de votos

los informativos favorecen al pnv nos damos cuenta de que en todos los meses del año aquí tenemos una suma de televisión y radio de que

alcanza casi casi el treinta por ciento de tiempo en antena es decir tiene el cincuenta por ciento más de tiempo del que en teoría le correspondería en proporción directa a su número de votos yo tengo estos datos creo que ustedes no han dado absolutamente ningún dato objetivo ni cuantitativo se han limitado

pero creo que los datos están para algo yo me fío del informe que hace mensualmente

cincuenta por ciento del tiempo que le correspondería por su representación política bildu tiene un cincuenta por ciento

el pp tiene el cien por ciento más de lo que le correspondería y el psoe y elkarrekin podemos con estos datos en la mano más o menos salen un punto arriba un punto abajo pero salen casi casi en proporción directa entonces yo lo que les animo es que cuando presenten este tipo de propuestas que todos los años que hay una de estas parecidas es una cosa de oficio

que apoye lo que en teoría no ha dejado de ser en sus palabras una opinión muy sesgada muy subjetiva pero que no la han apoyado con ningún tipo de cifras y claro decir que la información de una televisión pública

con hechos y con cifras y eso es lo que yo he echado de menos en su discurso besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

señora presidenta bien soy la primera mujer que interviene en este pleno en el día de hoy y quiero precisamente empezar reivindicando este día

popular hemos preferido reivindicar este día haciendo que se escuche nuestra voz en este parlamento y de hecho las dos representantes del grupo popular que vamos a intervenir en este pleno las dos somos mujeres respetando la postura y decisiones que hayan tomado las mujeres de otros grupos

pero que queda muchísimo muchísimo por hacer todavía hemos logrado mucho pero queda mucho trabajo

para conseguir romper ese techo de cristal para conseguir acabar con la brecha salarial

de condiciones en todos los ámbitos laborales culturales y políticos es un trabajo de todas pero también de todos debe ser un objetivo compartido y creo que todas las que hoy han hecho huelga y las que estamos aquí tenemos los mismos objetivos la igualdad plena y efectiva

nosotros hemos optado por reivindicar hoy aquí esa igualdad real que compete a toda la sociedad que nace

de ideas políticas y paso ya a la intervención de este punto y nuevamente en esta semana estamos hablando y debatiendo sobre e i te be una e i te be

políticos consideran que se han cumplido el setenta por ciento de los objetivos a pesar de encontrarnos con los peores resultados de su historia una e i te be en la que su equipo directivo considera que existe una gran conexión con la ciudadanía pero vemos que por ejemplo entre la ciudadanía euskaldun la audiencia no pasa del dos por ciento y ello a pesar de no tener competencia directa

directivo que vive en la autocomplacencia y que no duda en cargar contra la oposición contra los caníbales medios privados que pongan en solfa su brillante labor al frente del ente ellos no tienen la culpa

de los recortes presupuestarios y de los medios privados como se ha dicho aquí por parte del señor urruzuno en la ley de creación del ente se recogen como principios la objetividad

en las informaciones así como la distinción y separación entre información y opinión de verdad nos quieren hacer creer que se cumplen esos objetivos

de los teleberris están el resto de programas informativos de verdad estamos ante un medio objetivo e imparcial de verdad se distingue entre información

aquí y en otras ocasiones tanto por parte de este grupo como por parte de otros grupos que e i te be está instrumentalizada que es un medio al servicio de un posicionamiento político concreto con unos fines concretos uno más general al servicio de la ideología nacionalista y otro más particular el servicio del nacionalismo gobernante y por ello los informativos se utilizan con un fin muy concreto la propaganda

ocasión muchas veces parecen un nodo del gobierno continuos publirreportajes del gobierno los consejeros y el gobierno aparecen por los temas más nimios las noticias de grupos que no forman parte del gobierno los de la oposición tienen una cabida muy inferior

es clara las noticias no tienen como objeto informar sino como digo el autobombo continuo la venta de un país maravilloso en el que nunca pasa nada y si pasa la culpa es de madrid pero de quién es la culpa de que se llegue tarde a las noticias por ejemplo e i te be llegó tarde al

o llegó tarde a los atentados de paris en dos mil quince teniendo como tenemos un corresponsal en paris y otro en bayona por qué se llega tarde a las noticias cuando estas suceden entre las diez de la noche y las ocho de la mañana

a arrancar no en cero técnico como arrancamos en muchas ocasiones y a determinadas horas sino con una mayor audiencia por qué con los muchos y buenos profesionales pero no solo ahora señor ramírez en la época que gobernaba el partido socialista también y ustedes lo criticaban con los muchos y buenos profesionales que tenemos en la casa

de medios externos de programas externos programas estos en los que su alejamiento de posiciones objetivas también es claro como se decía aquí se mezcla información y opinión estos programas también son publirreportajes pero ahora a favor de otro posicionamiento no el del dar bombo al gobierno sino es una burda instrumentalización política a favor del nacionalismo y del independentismo y lo hemos visto

catalán cuantitativamente y cualitativamente ha sido absolutamente desproporcionado el tratamiento de e i te be

usted lo ha dicho de escasez de recursos y se incurrió en cuantiosos gastos para hacer programas especiales y para mandar enviados especiales a cataluña y cualitativamente la información tampoco ha sido objetiva en absoluto ha estado al servicio del procés e i te be ha actuado a modo de sucursal de te uve tres mostrando con profusión imágenes de independentistas

que estaban a favor de continuar en españa y en europa desde e i te be se trata de alimentar de jalear de insuflar ese sentimiento de independencia de los vascos haciéndolo además en un momento y lo he dicho en otras ocasiones en que ese sentimiento está más bajo porque lo que hace no es informar lo que hace e i te be y lo que ha hecho con cataluña ha sido adoctrinar

como el de la corrupción qué diferencia verdad si la corrupción sucede

se acuerdan de ese túnel que aparece en la película de ocho apellidos vascos

y con el tratamiento de la corrupción de e i te be de la entrada del túnel un tratamiento de los de la salida del túnel

caso de cargos y militantes del partido nacionalista vasco implicados en extorsiones y mordidas el cinco de marzo declaraba la testigo estrella portada en muchos de esos diarios caníbales como le llama la directora de e i te be la señora iturbe

teleberri dos minutos y medio teleberri uno teleberri dos dos minutos gaur egun

en jake trece minutos treinta segundos lo que está pasando tres minutos no le quiero ni decir cuáles han sido los tratamientos de otro tipo de corrupciones como dice la cuenta de twitter la mamba negra que le cito para reconocerle el copyright y porque además me parece muy acertado

una clase un ejemplo de manual de cómo esconder el caso de miguel sin ruborizarse sin ruborizarse al día siguiente

que es el tramo en el que se tiene menor audiencia diecinueve minutos

al final del programa en medio en medio se meten

eso es objetividad no qué era lo más cercano cuál era la corrupción que en teoría

cuál se pone y qué audiencias tiene usted ha hablado de las audiencias pues le voy a decir las del martes por ejemplo

la última cadena infantil e te be dos nueve coma tres e te be uno uno coma uno de audiencia la décimoquinta cadena vasca y estas últimas audiencias las de e te be uno

porque no tiene competencia porque sus informativos no tienen competencia porque sus programas

esos gestos no me haga esos gestos es la verdad no tiene competencia

sean euskaldunes y con eso tenemos un uno por ciento de audiencia y estamos absolutamente satisfechos si eso no es autocomplacencia vamos que venga dios y lo vea

vengo a vender mi libro y contestar pues ya si acaso para otro día verdad porque no se contestó a ninguna de la preguntas que se le hizo la oposición se nos quiso vender como un logro el incremento de las audiencias el dos mil diecisiete que vamos

pero es que el año dos mil diecisiete fue el segundo peor año en la historia de e i te be el segundo peor

es una razón absolutamente estructural es una razón absolutamente estructural en primer lugar es una televisión sin dinamismo sin originalidad que se limita a copiar los formatos de otras cadenas y que no se vuelca en lo que debiera ser su objeto

local y en segundo lugar porque su equipo directivo por cierto reprobado en esta cámara es un equipo como digo que vive de la autocomplacencia continua sin empuje y sin iniciativa mientras no hagamos como estamos haciendo

estoy de acuerdo porque no debemos olvidar que el noventa por ciento de esos casi ciento cuarenta millónes de presupuesto de e i te be los pagan todos los vascos y todas las vascas con sus impuestos

el concepto de objetividad y pluralidad que tiene su grupo y el que tenemos en el nuestro bien distinto pero ateniéndonos a lo que dice la iniciativa que es conseguir la objetividad y trabajar por la objetividad de los medios informativos de e i te be nosotros estamos de acuerdo lo que me extraña y lo que lamento señor urruzuno es que haya traído hoy aquí esta iniciativa a sabiendas de que se va a

o sea yo hoy aquí podría haber traído extractos de discursos de su compañero de la legislatura pasada señor unzalu y no lo voy a hacer porque ya viene siendo un clásico ya pierde su gracia también

sea ya es un clásico a ver yo lo que le pregunto a usted es qué es lo que ha cambiado en e i te be no lo que haya cambiado en el partido socialista eso ya lo sabemos qué es lo que ha cambiado en e i te be de pasar de una estrategia de acoso y derribo a e i te be a decir que todo

estamos hablando de qué es lo que está pasando en e i te be no de lo que estamos hablando en el grupo socialista

bueno por dónde empezar como nos han dicho ya

un apunte sobre la audiencia cuando hablamos también de que hay que utilizar variables cualitativas a la hora de medir las cosas quizás hay que plantearse que por ejemplo

a gente le interesa e i te be porque ofrece información local y porque a la gente le interesa ver las cuestiones que suceden

en euskadi en general no solo porque la información

y respecto a la medición de la objetividad ha dicho usted señor ramírez escudero que

es una nube misteriosa no la objetividad no es una nube misteriosa

existen variables indicadores diferentes tipos de estudios diferentes lugares de los que se puede tomar ejemplo para medir la objetividad yo no le digo que se vaya a medir el cien por ciento de la objetividad pero desde luego que existen variables para medir la objetividad

de quien haga las evaluaciones o en una nube misteriosa no es una nube misteriosa

ha hablado usted me ha leído usted unos artículos no voy a repetir ya algo que ha descrito

los gestores qué papel tienen en todo esto contestenos a la estructura de e i te be

como se funciona en esa redacción no solo eso sino que si además vamos más allá de los informativos lo que son puramente los informativos de e i te be el teleberri

los de las radios también existen como hemos dicho antes espacios de información política

que además generalmente están gestionados por productoras externas

estas productoras quién pide cuentas a estas personas

quién evalúa el contenido de lo que se dice en estos programas que dan información que son informativos que dan información política

con la cantidad de horas que llenan en e i te be este tipo de programas y están todos externalizados qué tipo de servicio público es ese

y luego también otro día si quiere hablamos del minutaje

y es verdad que hoy no hemos venido aquí a hablar ni de las cuotas ni de los minutajes me ha parecido curioso

que cuando usted habla de su partido no incluya la cuota que le corresponde al gobierno y diga entonces diga que tienen un quince por ciento y se olviden de lo que aparece el gobierno pero

cogemos esos datos objetivos que usted ha planteado que a nosotros ha dicho bueno que estamos a la par por no comentar mucho porque sabe usted cuáles son los datos y si quiere los tramos aquí que todo el mundo sepa cuáles son

cada partido político pero voy a poner un ejemplo nuestros diputados en el congreso de los diputados

siendo la primera fuerza en las elecciones al congreso dos veces

en los informativos de e i te be ni aparecen la primera fuerza en las elecciones generales ni aparece en los informativos de e i te be

eso por ejemplo pero bueno por finalizar en lo que se refiere a la medición de la calidad y de la información de e i te be objetiva y subjetiva

se trata del tratamiento informativo que se le da

un ejemplo muy gráfico usted ha intervenido diez minutos antes evidentemente ha sido subjetivo y ha planteado una posición de parte como le corresponde como portavoz de un partido político pero si yo cojo como indicador los minutos que usted ha intervenido y la audiencia

no puedo saber ni medir ni la calidad ni la objetividad de su intervención con esos datos

se nos presenta los minutos se nos presenta la audiencia se nos presenta la hora de emisión y se supone que con eso se cumplen

y objetividad que se le presuponen a un informativo por lo tanto dejen de pensar en e i te be como una empresa piénsenlo como un servicio público que es lo que es y al final conseguiremos tener una televisión pública decente

a nosotros no nos gustaba la anterior legislatura ni la anterior cómo funcionaba la e i te be y nos sigue sin gustar

se lo he dicho por eso nos empeñamos desde el arranque de esta legislatura en apostar por una reforma estructural e integral de e i te be cosa que fue desdeñada por este parlamento la anterior legislatura

hasta que ustedes oh sorpresa decidieron cambiar de pareja ustedes explicarán por qué hicieron ese cambio y ese giro pero lo hicieron no se sabe por qué intereses

se dé porque consideramos que la actual dirección y el actual consejo

en la ponencia para que se consiga de verdad que los profesionales de la casa apuesten de verdad por la pluralidad sin interferencias por parte de nadie eso es lo que pedimos en cada reunión

que se celebra y apostamos por algo que nos parece bastante más importante

y no nos parece mal nos parece que para elegir a un nuevo director y a un nuevo consejo se necesitarían mayorías cualificadas

y una duración que exceda del ámbito de la legislatura para que no esté sujeto al vaivén político o a la simpatía política del momento y tenemos tal convicción

que desde el pleno de política general fijamos esta reforma como una de las tareas ineludibles de este curso para conseguir una gobernanza más transparente y menos politizada

sean tomadas en consideración por esta dirección interina como aportaciones para mejorar pero esperamos también que nadie utilice esta excusa para bloquear
la reforma que es imprescindible que hagamos eskerrik asko

yo les pediría simplemente a elkarrekin podemos al pp y a bildu que no juguemos a periodistas que dejemos que los periodistas

esto es como el fútbol es muy fácil saber más que el entrenador es muy fácil ver un informativo y decir yo habría empezado con otra noticia pero hay que ponerse también en la carne y en la piel de los que

el orden de prioridad de las noticias cuál encabeza el informativo cuál tiene más tiempo cuál tiene menos tiempo

independentista catalana al margen de que su principal accionista señor roures tenga lo que tenga pero la sexta como tal es una emisora centralista le dedicó muchísimo más tiempo

era el eje informativo que interesaba a toda la gente luego habrá que ver si se pasaron si no se pasaron pero vamos

en que cataluña fuera independiente y estaba todos los días haciendo en directo todos los programas por qué

de la calidad y la objetividad son muy difícilmente mensurables en el tema de cataluña la señora llanos piensa que e te be dos tiró la casa por la ventana yo creo que respondió a lo que los informativos pensaban que era de interés de los oyentes

pueden ser los que más adornen este debate

un medidor o un concepto que pueda decir si la calidad es o no es si la objetividad es o no es el tiempo sí lo puede hacer respecto al tiempo el otro día no sin cierto humor el señor estarrona decía el lunes en la comisión de e i te be que estaba cansado de ver cómo el sailburu de sanidad inauguraba mamógrafos hay tanto mamógrafo en euskadi como para que esté todos los días

que invierte es un gobierno que todas las tardes inaugura visita fábricas y evidentemente los tienen que hablar de lo que hace el gobierno vasco claro partidos que no tengan ni diputaciones ni ayuntamientos en las ciudades importantes ni gobierno vasco evidentemente

el que invierte el que inaugura y eso corresponde al gobierno vasco me he dejado ahí arriba los datos pero también en el dato cuantitativo que nos manda la dirección de e i te be todos los meses también aparece lo que se dedica al gobierno vasco

que quizá esté sobre valorado el gobierno de madrid que tenga tanto como la mitad de tiempo de lo que hace día a día el gobierno vasco

que ha estado llevando acabo la política que llevó entre madrid y en la radio televisión valenciana hombre después de esos dos casos no nos venga usted a dar lecciones de objetividad porque

de vergüenza ajena y nada más simplemente repetir lo que he dicho antes datos datos y datos aquí se puede venir

venir a hablar de poesía pero si venimos hablar de una cosa que nosotros pensamos que no está bien hecha hay que armar el discurso con datos porque si no es la objetividad podemos hablar de lo que haga falta pero claro todos esos pensamientos subjetivos

no son descalificaciones a un ente son descalificaciones a trescientos personas que trabajan todos los días allí y que están representadas en un consejo de redacción usted hablaba de los gestores los gestores son un escalón más en la cadena de mando de los in formativos

hasta ahora había el dueño del periódico el director y los esclavos y a partir de ahí empezaron ya a introducirse a los periodistas en la gestión

desmontarlo cuál es la alternativa al consejo de redacción si tienen alguna plantéenla pero yo creo que no va a ser ni objetiva ni mejorable y luego lo que he dicho al principio dejemos que los periodistas hagan su trabajo no queramos jugar ni a editorialistas ni a redactores jefes ni a directores que es muy fácil pero es muy poco práctico besterik ez

ha corroborado usted lo que yo decía en mi intervención por qué no salimos señor martínez señor urruzuno por qué no salimos porque no gobernamos quién sale el que gobierna

qué es etb qué son los servicios informativos de etb un instrumento al servicio del gobierno

no salimos no salimos lo ha dejado usted claro

muchísimas gracias vamos después de su intervención ya nos queda claro quién sale y para qué sirven los informativos y usted habla de la profesionalidad

y en la época del señor surio dónde estaban cogieron la excedencia todos los profesionales

como partido nacionalista vasco de queja a e i te be por el tratamiento pues entonces nosotros tendríamos que mandar más cartas

porque el tratamiento que se le da usted habla de minutos oiga si es por minutos que dedican al partido popular igual se quejan el resto porque estamos sobre representados porque vamos o sea las noticias las malas eh las malas todas siempre y le voy a poner un ejemplo usted que dice datos le voy a poner un ejemplo

para presentar una iniciativa que íbamos a presentar en este parlamento periodista

qué salió la pregunta de bárcenas ahora si llego hablar del caso de miguel

y eso de verdad me quiere hacer ver que es objetividad y ustedes utilizan la ley del embudo la misma ley del embudo que utiliza la dirección de e i te be que es las audiencias verdad justificación cuantitativa y cualitativa del tratamiento de buuf es que dieron muchísima audiencia hombre encontraron ustedes su gran hermano particular

audiencia porque esos puntitos esas décimas que han subido

por cataluña y entonces claro hay que gastar y hay que

y entonces ya está justificado ahora

otros programas que no tengan audiencia no pasa nada no se retiran

que lo hace la siguiente vez se vuelve a contratar con ella porque la audiencia en ese caso no pasa nada no es un dato objetivo en qué quedamos la audiencia es buena cuando ustedes quieren

no es algo a tener en cuenta cuando no les interesa y hablan de medir

y pongo entre comillas lo del compromiso porque vamos con la deslegitimación del terrorismo es las noticias que se dan y cuando yo pregunté qué se incluía en ese relato hablaban de cataluña

que qué tendrá que ver con la deslegitimación del terrorismo y con

bueno pues eso es como ustedes valoran el cumplimiento de los fines

con el gobierno vasco y usted me dice que no se puede medir la objetividad y la imparcialidad

es muy difícil y teniendo el concepto que ustedes tienen de objetividad e imparcialidad

también y miren

nosotros sí que nos hemos mantenido siempre en la misma posición la que teníamos en la legislatura pasada es la que tenemos en esta

distintos puntos de vista porque usted habla de objetividad y de pluralidad pero nosotros por ejemplo ustedes no dijeron nada

se estaba anunciando la famosa cadena humana manifestación del gure esku y la

ese movimiento eso no es opinión lo pusimos encima de la mesa en el consejo de administración y a ustedes les pareció bien

cuando pusimos encima de la mesa el ataque a la pluralidad que supone llamar en un programa financiado con el dinero de todos los vascos y todos los vascos insultar a una parte de esta sociedad

y se le calificaba de chonis y de fachas a los españoles eso contra eso tampoco porque

de lo que se trata es de aplicar los mismos conceptos y los mismos criterios en cualquier caso y nosotros lo decíamos en la legislatura pasada y lo

además de mal gestionada además de no tener empuje además de no tener impulso además de no tener originalidad a e i te be le falta total y absolutamente

egun on legebiltzarkideok hoy en un día como hoy no voy a robarles

demasiado tiempo creo que la atención debe estar en otra parte pero sí que explicar brevemente

no de ley con la intención de intentar minimizar o intentar actuar sobre los problemas que está generando

directiva europea directiva bolkestein en el sector del comercio de la venta ambulante y más concretamente en lo que popularmente llamamos mercadillos y mercados

esta iniciativa es porque diferentes asociaciones

con nuestro grupo parlamentario o mejor dicho con grupos municipales de los tres partidos de nuestra coalición para

y la situación que consideran que están viviendo de incertidumbre para poder desarrollar con una mínima seguridad su trabajo del que viven su trabajo de venta

después de escucharles y de analizar la cuestión y conocer esta

alguna iniciativa finalmente hemos llegado a un acuerdo con los grupos que han hecho enmiendas a nuestra

original creemos que el acuerdo al que se ha llegado

positivo vemos que no es un gran gran acuerdo pero que es un acuerdo positivo y que va a permitir al menos

de cosas que puedan paliar esos problemas que se están encontrando las trabajadoras y los trabajadores

de la venta ambulante como ustedes saben estas trabajadoras y estos trabajadores

en diferentes localidades cada día de la semana trabajan en una localidad diferente y esta es una condición especial o que caracteriza a este sector de una manera especial y que les genera unas dificultades concretas a la hora de poder amortizar las inversiones que hacen los gastos que tienen para

sus pequeños negocios de los que viven y de los que obtienen

diferente con una normativa diferente puesto que la competencia a la hora de regular está en el ámbito algo que a nosotros nos parece bien pero el hecho de que tengan normativas diferentes en cada localidad supone que se tienen que atener a unas reglas diferentes cada día de la semana

cinco seis o incluso siete días a la semana para poder tener unos ingresos suficientes

una vida digna y por lo tanto dependen de cinco seis

normativas diferentes bien esto genera un problema o les genera un problema en concreto que es al menos la no armonización

de las adjudicaciones de estos puestos en los mercadillos les supone que un comerciante que tiene adjudicado el puesto en irún para los próximos cuatro años le puede pasar que el martes le toca ir a andoain pero en andoain tiene solo para dos años el miércoles va a donostia

para un año y así sucesivamente y por lo tanto a la hora de hacer la inversión es muy difícil hacer en unas determinadas condiciones de seguridad esa inversión porque no puede invertir a cuatro años porque en irún tiene un puesto garantizado cuatro años

y ello necesitan al menos para generar unos ingresos suficientes para la vida al menos

en cinco mercados a la semana bueno entonces nosotros pensamos

a través de diferentes instrumentos en nuestra iniciativa original hablábamos de la posibilidad de una ley a nosotros ya nos quedó claro por los grupos que nos enmendaban especialmente por el grupo del partido socialista que ellos no veían oportuno la ley de la que nosotros hablábamos

en banda y pensamos que también hay otras formas posibles de que se armonice esta cuestión porque sí que nos parece importante esa armonización y nos parece que esa

de la autonomía municipal y de la capacidad que deben tener los propios ayuntamientos a la hora de regular este tipo de cuestiones y ayudaríamos a estas trabajadores y estos trabajadores a tener una seguridad y una certidumbre a la hora de bueno de poder ganarse la vida con esta actividad

hemos alcanzado hablamos de paliar los efectos de la normativa a la que mencionado antes de la directiva europea la directiva bolkestein que es una directiva europea a la que

nuestro grupo bueno podemos y en aquel momento no existían pero

hicimos una serie de consideraciones porque sabíamos los prejuicios que iba a tener para nuestra sociedad esta directiva y en este caso concreto en el caso concreto

que efectivamente los efectos también en este sector son perjudiciales para un sector de trabajadoras y trabajadores que se levantan

muy temprano para poder ganarse el pan

con una actividad que tiene un carácter especial y que nosotros creemos que tenemos que atender también de una manera no de una manera privilegiada pero de una manera especial porque tiene unas características especiales bien nosotros hemos llegado a un acuerdo de transacción

en los términos que he expuesto que el gobierno tiene que realizar una serie de medidas concretas y sobre todo creemos que tiene que hacerlo teniendo en cuenta la opinión

es que no se les suele tener en cuenta y de manera especial lo entendemos si se deja toda la responsabilidad de este asunto en manos de los ayuntamientos entendemos que quizás el gobierno hasta ahora no ha tenido a bien contar con este sector por lo tanto nosotros lo que finalmente se ha acordado

del sector contando con la opinión de estos profesionales así como de otros que tengan que ver con el asunto sindicatos etcétera y lógicamente con los propios

y en segundo lugar que el gobierno en la aplicación y en el desarrollo y elaboración de estas medidas los haga también bajo un criterio que tenga el objetivo de minimizar esos efectos negativos y perversos que esta directiva europea está suponiendo

creemos que se ha llegado a un acuerdo positivo nosotros

les anuncio que mi grupo va a seguir estudiando otras

que puedan plantearnos iniciativas para traer a esta cámara

de este sector vamos a seguir estudiando la posibilidad de la ley porque nosotros no descartamos la posibilidad de que tengamos una ley de este tipo en otras comunidades la tienen y el sector la considera positiva y por lo tanto

plantear una ley de este tipo sin perjuicio de la autonomía de los ayuntamientos por lo demás agradecer a los grupos con los que hemos

intención es que la venta ambulante sea una profesión

rentable y que pueda ofertar estabilidad y un modo de vida digno y estable a las personas que lo desempeñan para eso es importante que haya un marco regulatorio que permita que esto suceda así y que no suma en una permanente inestabilidad

entendemos que es importante sentarse a hablar y acordar entre todas las partes implicadas

para respetando el reparto de competencias actual y la legalidad vigente al respecto sí buscar las fórmulas más adecuadas para aportar a este sector

de profesionalizarse la posibilidad de realizar inversiones a medio plazo que evidentemente requieren luego unos plazos de amortización que solo pueden existir si hay estabilidad dentro del sector etcétera etcétera por todo ello creemos que esta es la aportación que vamos hacer modesta aportación pero que creo que puede poner

y nos congratulamos efectivamente de que haya sido posible este acuerdo
por la voluntad de todos los grupos eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

presidenta señorías en primer lugar expresar mi solidaridad con las mujeres y especialmente con las que hoy luchan por la igualdad y también aclarar que las compañeras de mi grupo parlamentario solicitaron a la mesa del parlamento el descuento directo del salario de este día técnicamente no es posible y ellas decidieron donarlo a una función social que asimismo determinarán

creo que estamos ante un debate que tiene su interés su importancia económica social y de servicios en el país vasco y quisiera puntualizar antes de llegar a las conclusiones algunas cosas se nos proponía de inicio que hiciéramos una iniciativa legislativa desde el gobierno un poco en contraposición a lo que ha sido

europea sobre la regulación del sector del comercio ambulante nosotros de inicio como pudimos reflejar en nuestra enmienda

no veíamos necesario ni conveniente entrar en una confrontación legislativa

ya ha tomado una decisión y que nos vincula y cuando además la competencia de regular todo esto recae en los ayuntamientos función que queremos que siga siendo

el comercio ambulante tiene una expresión muy diferente en cada uno de los doscientos cincuenta y uno municipios del país vasco

con un desarrollo comercial con otro y todo esto obviamente les corresponde a los ayuntamientos organizarlo para que esta función de servicio que hace el comercio ambulante

de los ayuntamientos sin embargo es cierto que el sector al tener una regulación europea sí de alguna forma en un intento de dar

ha limitado a un sector una expectativa porque abriéndolo lo que hace es también cerrarles las posibilidades y por lo tanto si no hubiera ningún tipo de regulación si no hubiera ningún tipo de límite pues estaríamos ante una liberalización pero todo el mundo estaría en igualdad de condiciones cuando a un sector se le pone un tope ya

marcando una limitación bueno esto es importante que podamos y que podamos intervenir pero hay que decir también como puntualización que el sector del comercio ambulante en el país vasco no es un sector que esté olvidado por la acción del gobierno y que el programa hirigune del gobierno vasco ya viene desde hace mucho tiempo desarrollando acciones que por un lado

áreas urbanas para desarrollar este comercio ambulante por otro lado hay subvenciones a unidades móviles del negocio a unidades fijas a elementos sanitarios a elementos de calidad a elementos de promoción bueno hay de actividades de iniciativas que están en colaboración

ayuntamientos y que viene funcionando y también por precisar hay que decir que si uno coge

se dará cuenta que más allá de la directiva europea y de la regulación que poco a poco se va haciendo en algunos ayuntamientos y que en otros todavía no se ha hecho para adaptarse a esa directiva

en número de negocios ambulantes como en trabajadores que viene ser a la par estamos hablando de unos

y algo más de trabajadores hace diez años y sin embargo de setecientos aproximadamente en la actualidad por lo tanto es más las circunstancias económicas

las que han intervenido en cómo ha ido debilitándose este sector que

de estas precisiones y de estos datos compartimos la preocupación de atender más y mejor respetando la competencia que cada uno tiene y por eso en vez de ir a hacer una ley y entrar en una confrontación a un encuentro a una colaboración a que el gobierno vasco tenga un lugar de encuentro con los agentes comerciales sociales que están afectados por el comercio ambulante con los propios ayuntamientos porque son los

las regulaciones y que se pudieran armonizar algunas medidas algunas ideas para que haya una mayor estabilidad para que haya unos periodos de amortización más largos y que merezca la pena la acción

y también para que eso obviamente pueda convivir con otros sectores de la economía como el comercio de establecimiento donde también hay emprendedores también hay situaciones de autónomos también hay otras

que convivir y que sabemos que en alguna medida aquí existe una competencia no es posible vascular mucha protección hacia un sector

no es tampoco razonable entrar en campos de discriminación competitiva y

esto es lo que hemos hecho en la enmienda transaccional que cuenta de entrada con una

aceptación por parte de esta cámara yo creo que este va a ser un paso adelante para poder hacerlo con tranquilidad con normalidad y sin entrar en conflictos jurídicos

un impulso y una armonización del sector ambulante y

o encontrar espacios de colaboración y de agrado para todos para que

importante con un emprendimiento importante con trabajadores que se ganan la vida así y también con una atención desde el punto de vista del servicio a aquellos ciudadanos y ciudadanas

de cuál es su potencial económico y de servicios en esos lugares y por lo tanto muchas veces este servicio tiene mucha más importancia que el del consumo directo sino es también el del acercamiento y el de la facilidad

sus necesidades y hábitos de consumo

egun on guztioi hoy es un día reivindicativo y eso está muy bien sobre todo por la reivindicación que es pero esa reivindicación está convirtiendo el orden del día de este parlamento yo diría que en un día de restos de serie especialmente en el asunto que estamos tratando

relativo a la directiva comunitaria de servicios conocida como directiva bolkestein que por cierto

ya había dejado de ser comisario cuando se aprobó esta directiva pues

viejuno otra cosa es que pueda afectar que no sé tanto a determinado sector pero para empezar esa directiva se aprobó en dos mil seis

es decir se aprobó hace doce años y entró en vigor en el dos mil nueve hace nueve años

en mayo del dos mil diecisiete ocho años después

directiva y como estaban muy urgidos para debatirla en este parlamento pues simplemente han esperado diez meses para hacerla visible en un pleno dicho esto y como los motivos por los que aquí ha venido el tema ya han sido expuestos por el proponente

que mucho más reciente que la directiva y muy poquito anterior a la presentación de esta pnl

solo un año antes se aprobó en este parlamento la ley de instituciones locales de euskadi esta ley

propias transferidas o delegadas y ya en el artículo diecisiete dice cuáles son las competencias propias de los municipios ni delegadas ni nada propias y en su apartado treinta y cuatro cito textualmente ordenación

interior en concreto lo relativo a la ordenación y gestión sobre mercados abastos ferias lonjas mataderos y comercio ambulante incluyendo igualmente la planificación y ordenación del uso comercial al por menor

equipamientos comerciales atendiendo a criterios de ordenación urbanística

y utilización racional del suelo dicho esto

que no es otra cosa que asesorar a ayuntamientos y efectivamente poco después de la aprobación de la ley de entidades locales los departamentos de agricultura y salud

cita esto en la explicación de su pnl cita que es un

hacen un documento para intentar explicar ayudar a los ayuntamientos

y deja bien claro todo el tiempo que es una guía formativa e informativa no puede entrar a mayores es lo que toca en la que entre otras cosas

por parte de los ayuntamientos y según lo establece la directiva

tienen que ser necesarios proporcionados y no discriminatorios y entre todos seguramente estamos de acuerdo en que los principios generales de cualquier concesión pública deben de manejar estos conceptos y partiendo de esos principios el resto ya le corresponde al ayuntamiento

lo que inicialmente se hizo con este pnl no fue otra cosa que proponer

a cuando el gobierno central realiza leyes con intención normalizadora del estado y se carga las competencias que le son propias a euskadi no puede ser que allí no y aquí sí porque alguien piense que es una superar necesidad en un momento determinado porque alguien

y más cuando la directiva a la que apelan es de hace doce años le vuelvo a insistir y la ley que han querido con la inicial pnl cargarse es de hace solo dos años

que eh bildu también en su enmienda pidiera una ley

para quitarle una competencia a la administración local cuando esa ley la habían apoyado ellos entusiásticamente y la trabajaron a fondo para poder

no sé por la vía de una directiva que ustedes entienden que hay que cargársela y por tanto

me cargo la competencia de los ayuntamientos la dignidad y estabilidad de los ayuntamientos como ha dicho el señor casanova está garantizada si los ayuntamientos lo hacen bien por cierto además ustedes tienen un montón de ayuntamientos en este país

entendamos que son administraciones que hacen bien las cosas y que tienen criterio para hacer las cosas no podemos quitarles una competencia porque creemos que alguien dice que lo han hecho mal a ver en conclusión el tema es competencia de los ayuntamientos y el gobierno respeta la autonomía municipal y la ley de instituciones locales y en la medida que pueda colaborará evidentemente que colaborará ya está colaborando

siempre respetará la ley municipal

y no intentará hacer una ley para quitárselas otra cosa es apoyar

en la profesionalidad y en un tema que hoy hasta ahora no había salido que es la defensa del consumidor que también es muy importante en todo el aspecto comercial pero también de la venta ambulante al tiempo

más que de la directiva bolkestein que tampoco es de nuestro gusto

le dio un trueno y decidió liberalizarlo todo es una aplicación en directiva comunitaria de sucesivas sentencias del tribunal de justicia de la unión europea que

y de servicios en europa y sucesivas sentencias revocaban esas negativas de autorizaciones

también hay que ser justo en ese tema y podríamos hablar también de lo que usted llama y a mí me produce temblores menos mal que ya en la transacción no ha quedado

la armonización es un arma de doble filo la armonización es un concepto que por ejemplo se utiliza cada vez más

hay que andar con mucho cuidado con la expresión que se utiliza

con la armonización no puede usted quitar las competencias a los ayuntamientos como podemos hablar de cuando en su propuesta inicial habla

ese es un modelo en el que en principio lo ambulante lo convertimos en sedentario es un tema a debatir pero dicho lo dicho y especialmente ratificado nuestro respeto a una ley recientemente aprobada

bueno pues realmente nos satisface haber llegado a esta transacción que resuelve de una manera razonable lo que ustedes de entrada proponían y que termina por apostar por el mantenimiento del marco competencial de las diferentes administraciones ya no creo que resulte necesario gastar más neuronas de las necesarias en un tema que ustedes mismos en principio habían dejado arrumbado y lo han rescatado exclusivamente

poder darle contenido a este pleno porque le vuelvo a repetir

y es una directiva anciana hasta el tiempo que se han tomado para activarla en el pleno es decir

satisfechos con lo que hemos llegado simplemente simplemente por terminar y porque me quiero permitir hacer un homenaje a un amigo mío que

traigo a colación un par de aforismos del que él era muy aficionado y publicaba aforismos suyos sobre el tiempo

pues todo lo que hemos hablado en este presente es más del pasado

siempre acaba pasando es solo una cuestión de tiempo la vida fluye desde el futuro hacía el pasado porque empieza cuando todo es futuro
y acaba cuando todo es pasado muchas gracias eskerrik asko

buenos días señor lehendakari señores consejeros señorías

nuestro grupo no hizo enmiendas a la iniciativa original

como ya se ha recordado aquí se pedía en el primer punto se instaba al gobierno vasco a que elabore un proyecto de ley

un segundo punto en el que pedía aumentar en quince años las autorizaciones municipales para ejercer la actividad de comercio ambulante

servicios públicos de la unión europea nosotros íbamos a votar en contra de esta iniciativa y es verdad que vamos a votar a favor de la iniciativa

no coinciden en nada señor hernández han renunciado a lo que presentaron y es que señorías

de mil novecientos noventa y cuatro de veintisiete de mayo de la actividad comercial donde el título tercero de la ley habla de las modalidades y prácticas especiales de venta

realizadas fuera del establecimiento comercial permanente y desde el artículo catorce hasta el artículo veintitrés se habla de

en regular la venta ambulante de los territorios es decir antes de la ley

del año dos mil dieciséis ya tenemos una ley que recoge esas competencias por lo tanto tenemos una ley que regula

que es muy importante y además dice que la vigilancia y control les corresponde hacer a los ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las normas

y ordenación de la actividad comercial así como el control y sanción de las infracciones leves y graves sin perjuicio de las competencias

por tanto tenemos regulado esto en una ley y esta ley se modificó en el año dos mil ocho porque fuimos nuestra comunidad autónoma fue muy ágil a la hora de adaptar nuestra normativa

y se aprobó la ley siete barra dos mil ocho de veinticinco de junio sin perjuicio de lo que luego diría

el real decreto del dos mil diez y la ley de dos mil dieciséis de administraciones locales por lo tanto la venta ambulante está regulada en esta comunidad autónoma y deja en manos de los ayuntamientos la competencia para

y la administración como ya se ha dicho aquí pero es que además dice algo más dicen que la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria tendrá una duración

fijará la duración de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria previa ponderación de la amortización de la inversión efectuada y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados

el procedimiento de concesión debe ser público y transparente de forma que a pesar de que las autorizaciones tengan una duración limitada en el tiempo se proporcione como he dicho antes un resarcimiento justo de las inversiones acometidas por sus titulares

por lo tanto son los ayuntamientos los que dan esa autorización y la autorización como hemos dicho tendrá

de vigencia limitado por distintas circunstancias según las solicitudes es que hay mercadillos de un fin de semana al año es que hay mercadillos de un mes al año es que hay mercadillos de días fijos por semana pero es que las circunstancias son

pudiendo ser anual o no o superior o no y como he dicho anteriormente teniendo en cuenta la inversión que los

para ajustarse al modelo determinado desde el ayuntamiento

las autorizaciones podrán ser revocadas por la alcaldía cuando lo considere oportuno eso se dice también en la ley del dos mil diez

atendiendo a diversos aspectos cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento se ha suspendido el mercadillo por circunstancias

por necesidad de reordenar los servicios públicos por otras causas de interés público que convenga su suspensión

por lo tanto conceder una autorización para quince años

dejaría de ser una venta ambulante y sería una venta sedentaria con lo cual

también de igual manera se podrá proponer el traslado provisional o la reubicación provisional de puestos en esas circunstancias quiero decir que puede haber que se suspenda el mercado o que se

o no por lo tanto señorías yo creo que estamos ante una situación que es una actividad

es ambulante y no sedentaria y está sujeta de ciertas movilidades es verdad que la administración tiene

pero estará usted conmigo que está sujeto a una organización de la administración local y por lo tanto puede haber circunstancias en las que eso se varíe en cuanto a la guía que se ha hablado aquí pero que a mí me parece una guía

y que es buena para la administración el ayuntamiento en este caso

porque efectivamente hay unos aspectos que no están ni en los decretos ni en las leyes y a veces en las ordenanzas no se recogen de manera explícita algunos aspectos y estamos hablando de las

derechos de las personas consumidoras y usuarias estamos hablando de principios generales

de higiene de presentación y etiquetado de los alimentos de alimentos prohibidos y de alimentos desaconsejados

de los puestos de venta también en definitiva es una guía muy didáctica y creo que es un manual bueno para esta actividad y sería bueno que se divulgara y que la conocieran todos los

del comercio de la comunidad autónoma pero hay mucho mercadillo donde vienen comerciantes ambulantes

zonas que no son de la comunidad autónoma y eso también sería bueno divulgarlo y que tengan conocimiento de cómo tienen que operar aquí y en qué circunstancias

que han acordado o que he visto que han acordado ustedes nos parece bien siempre se puede contribuir y perfeccionar algunos aspectos dar seguridad a los comerciantes ambulantes pero desde luego ustedes han renunciado a una nueva ley han renunciado a los quince años

la verdad es que nosotros no hemos renunciado a nada

varios de los planteamientos que hacíamos pero ya he dicho en mi anterior intervención

estudiando la posibilidad de una ley que nosotros defendemos periodos adecuados y en la enmienda de transacción no se habla de quince años pero sí se recoge que se tiene que atender al problema de los plazos y ese es el problema

porque es verdad que puede ser quince puede ser otra pero hay un problema de plazos

a la directiva bolkestein en general y a cómo afecta a este colectivo pues nosotros la mantenemos y la vamos a seguir reivindicando aunque no

yo creo que es demasiado presuponer que cuando y desde luego no lo comparto y no es así que cuando nosotros planteamos la posibilidad de una ley lo estamos haciendo

su opinión desde luego esa no es nuestra intención la señora lópez de ocariz dice que ya hay una ley que afecta

por lo tanto entiendo que esa ley no va en detrimento de la competencia municipal y por lo tanto el hecho de que se plantee

no tiene porqué necesariamente afectar a la competencia municipal creo que ha sido un argumento absolutamente desacertado y desde luego no era intención nuestra cuando proponemos la posibilidad de una ley atacar al ámbito municipal porque además desde luego nosotros también y

siempre se han definido como municipalistas bien yo creo que el acuerdo es bueno

hay que hacer alguna serie de cosas creo que yo en mi intervención

hemos hecho ninguna especie de crítica que el gobierno haya desatendido a este sector o que el gobierno no haya hecho nunca nada con respecto a este sector por eso no entiendo muy bien

llegado a un acuerdo que pone en primer lugar encima de la mesa un problema que hay un problema que tienen estos comerciantes de este sector al que hay que darle algún tipo de respuesta nosotros realizamos esta iniciativa es verdad hace bastantes meses

cuando se puso en contacto con nosotros varias asociaciones de comercio ambulante

de la comunidad y la hemos traído al parlamento cuando nos parece oportuno y eso no quiere decir que nos parezca una cuestión

para todas las iniciativas que se traen porque ya he oído varias veces en esta cámara no solo a nuestro grupo a diferentes grupos esa especie de consideración de que cuando se registra una cosa y se lleva un año después eso parece que es que tiene menos valor

trae a debate una cuestión en un determinado concreto para mí esta cuestión no es menor reconozco que puede haber cuestiones de mayor

en este sector tiene una importancia de manera particular yo me he criado yendo los sábados al mercadillo de irun todos los sábados y yo veo a esta gente cómo trabaja

menor y por eso además hemos llegado a un acuerdo para poder avanzar

y estos trabajadores establecer determinados periodos sean de diez o de quince años no hace que esta actividad deje de ser o se convierta en sedentaria como han dicho ustedes precisamente porque es que cada día trabajan en un sitio aunque tengan un permiso de diez o de quince años el lunes van a tener que ir a un pueblo pero el martes van a tener que ir a otro y ese pueblo mismo donde tienen diez años van a tener que volver el lunes que viene van a tener que montar y desmontar todos los días

en sedentario porque los periodos sean de dos de cuatro de seis o de ocho años yo no he entendido muy bien ese argumento bueno en cualquier caso gracias a los grupos firmantes gracias también al partido

a votar a favor de la transacción eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

en vista de algunas alusiones o algunas cuestiones que se han planteado aquí pues

por matizar yo al señor tellería le recomendaría que guardara la artillería para batallas más importantes y no porque este tema como decía el señor hernández sea menor

acordado que hay una resolución en la que su grupo es partícipe y quizás el tono y la agresividad se deba reservar para otros momentos yo creo que usted

la ley orgánica de armonización del proceso autonómico y piensa que vamos a hacer

porque este es un tema que efectivamente genera una problemática muy concreta la ley de instituciones locales obviamente le da la competencia a los ayuntamientos pero sin intentar invadir ni recuperar esa competencia sí que es cierto que hay que buscar una formulación que le ofrezca a los diferentes ayuntamientos la posibilidad de

una respuesta más o menos homogénea a una realidad

a gente que va rotando por esos municipios pues sería más interesante que sin ningún menoscabo sin ningún desdoro sin ninguna recuperación de competencias se le pudieran plantear a los ayuntamientos una serie de criterios comunes

y lo que planteamos es que se mejore lo que se ha hecho es cierto que esto quizás no tenga que tener la formulación de una nueva ley

transaccional rectifica la propuesta de que esto se haga mediante una ley y lo que hace es que se propongan una mesa de diálogo en la cual se puedan buscar esos criterios comunes yo entiendo que los ayuntamientos tienen competencias muy amplias lo decía la señora lópez de ocariz que no habíamos hecho alusiones a la comercial sí hemos hecho alusiones a esa ley precisamente al decir que hay cinco artículos que

por la ley de modificación que venía a responder a la directiva

que es muy prolija y necesita regular muchas cosas en detalle ahí efectivamente tiene que haber un ámbito muy amplio en el cual el ayuntamiento decida en que días no en qué zonas sí en qué zonas no efectivamente todo eso es competencia municipal pero una serie de criterios comunes que se pueda ofertar a los ayuntamientos para que los compartan

no tenga que hacer una adaptación diaria en determinados aspectos y eso yo no creo que sea ni una loapa ni una recentralización ni quitar a los ayuntamientos las competencias y como ya

a la guía hecha por el gobierno vasco las diputaciones desde el

la propia eudel ha presentado un modelo de ordenanza para que los ayuntamientos tengan más fácil el poder abordar una problemática que puede ser compleja y para la cual les puede resultar útil tener un modelo

evidentemente no han tenido mucha voz hasta ahora que son los propios profesionales del sector

a un punto de acuerdo y de sincronización o de homogeneización legislativa se llegue y a partir de ahí que cada ayuntamiento la pueda desarrollar

de sus competencias que nadie está tratando de recuperar y una última cuestión sobre la directiva bolkestein también parece que es fruto de una especie

o la interpretación del tratado de la unión llevaba indefectiblemente a que se aprobara una normativa como la normativa bolkestein y eso no es así es cierto que había sentencias y que había tratados

por determinadas prácticas que podían restringir la competencia pero la propia trayectoria de la directiva bolkestein demuestra que se puede hacer de una forma o de otra

que aun así sigue siendo bastante liberalizador es decir no hay un determinismo que nos obligara a tener la directiva bolkestein tal y como está sino que es fruto de una correlación de fuerzas

que llevó hacer una ley liberalizadora y derechista y eso es lo que tenemos y lo padecemos y lo padecemos en este tema y como decía

determinar cuántos centros comerciales queremos tener o dónde queremos implantarlos o qué dimensiones tienen que tener como nos ha pasado con el plan territorial

si la directiva bolkestein la aplicaran

dentro del periodo que se concede a la venta ambulatoria por un año haría totalmente inviable el sector y estaría dentro de la ley a veces

efectos delicados perversos nocivos como se quiera denominar que hay que atenderlos

sin contravenirla se puede paliar efectos negativos que pueda tener yo creo que este es el principal argumento de la iniciativa que estamos llevando acabo yo no sé ustedes cuánto visitarán los mercadillos yo lo suelo hacer mucho sobre todos si son de antigüedades y lo hago mucho

yendo a mercadillos de antigüedades siempre están los mismos y no sé cómo aplican en francia la directiva bolkestein pero siempre están los mismos yo creo que deberíamos de hacer algo que

europa con francia y con el país vasco y que genere una facilidad para que este sector pueda seguir con su actividad

no suele ser usual hacerlo en el parlamento pero yo le quiero agradecer al señor hernández que haya renunciado a ciertas cosas

en el aspecto partidario sino a la hora de poner en conjunto su iniciativa en esta cámara hoy podíamos tranquilamente haber acabado este debate con una votación cada uno de su posición para que finalmente no saliera nada bueno

sabía que tenía que modificar algunas de sus pretensiones y como me parece que una cámara vasca que representa a la ciudadanía vasca

sino para producir algo en beneficio a los ciudadanos que representa creo que hoy hay un acuerdo que permite trabajar y avanzar y le da interés y eficacia a este parlamento y por lo tanto

que alguien sea flexible para que se genere finalmente un consenso me parece

y un desatino eskerrik asko prieto jauna

egun on berriro como los demás tampoco quería salir pero no sé se ve que un tema como este ha suscitado

hacer un debate parlamentario sobre un tema que por cierto

avanzado y que hayamos transaccionado si cada uno se hubiera mantenido en la suya

nada no hubiera salido la nuestra hoy hubiera salido la nuestra teníamos mayoría

y lo mismo que yo respeto que cada cual traiga

lo respeto pero me llama la atención que en un pleno como hoy todas las que han venido

han retirado son de hace diez meses de mayo todas no una

todas eran estaban arrumbadas porque había pasado un tiempo y no las activaban lo mismo yo respeto que me dejen ser artillero cuando quiero ser artillero y

usted me conoce muy bien puedo sacar el bazzoka cuando quiera y lo de hoy ha sido vamos una cosa de niños

no otra cosa es que bueno también todo depende de el interlocutor cómo tome los balazos

insisto me ha llamado la atención me llamó la atención como ustedes en su enmienda pedían una ley que en el fondo es verdad modificaba la ley de entidades locales lo hacía cualquier ley que se quiera hacer

ambulante modifica la ley de entidades locales porque le vuelvo a repetir la ley de entidades locales en el artículo habla de ordenación y gestión

que intentemos buscar acuerdos los ayuntamientos son los primeros que están buscando que les asesoren que les digan cómo hacer las cosas y eso está muy bien y que si eso permite que todo el mundo más o menos haga lo mismo pero tenemos ayuntamientos muy diferentes mire yo soy concejal en un ayuntamiento que tenemos el día de venta ambulante los viernes y andamos locos porque no viene nadie

y me imagino que el primer lunes de gernika el ayuntamiento de gernika está loco porque todo el mundo quiere ir ahí porque hay mucha gente

es muy complicado en los pueblos pequeños queremos que vengan más vendedores y no se nos ocurre

para que nos de servicio a los ciudadanos de pueblos pequeños no puede ser es decir que

y la armonización yo simplemente he dicho la armonización cuidado con ella cuidado con ella utilizar esa expresión eso no ha sido artillería eso ha sido fueguitos artificiales señor casanova

en eso no y en cualquier caso agradezco de nuevo la transacción pero voy a anotarles una cosa cómo estaban dejando a los ayuntamientos ayer a última hora cuando estábamos tratando la transacción en el punto en el que se dice

escuchando a los vendedores a los comerciantes se habían olvidado

y lo tuvimos que añadir lo añadí yo y eso

que por muy municipalista que sea en este tema se ha ido olvidando un poquito a los ayuntamientos veo que al final ha firmado ha transaccionado y por tanto todos nos estamos acordando de los ayuntamientos que tienen su vida tienen su política tiene su actividad

en el punto anterior pero bueno aunque aquí aunque uno tenga un acuerdo pues nunca se sabe así que

nos dicen es una herramienta central para el ejercicio del derecho de ciudadano a participar activamente en la transición energética

y menor será su coste es solidario con el medio ambiente al evitar el uso de fuentes de energía contaminante y la emisión de gases de efecto invernadero contribuyendo a la mejora del aire es solidario con el país

equilibrando la balanza comercial y mejorando la soberanía energética es solidario con el resto de consumidores

el precio de la electricidad y la factura de la luz para todos los consumidores

al pagar los costes del sistema por tener derecho a usarlo el autoconsumo genera competencia y aumenta la flexibilidad en el sistema eléctrico lo que puede también derivar en reducción de precios finales de energía aporta beneficios al sistema eléctrico al evitar pérdidas al sistema ya que se acercan el punto de producción y el punto de consumo y también evita el desarrollo

será imprescindible un desarrollo de la gestión activa de la demanda y en este sentido también el autoconsumo es un gran aliado al ser una herramienta de empoderamiento del consumidor facilitando la entrada de nuevos

y aplanando la curca de demanda no implica coste adicional alguno para el sistema eléctrico

sin necesidad de ningún tipo de ayuda y el autoconsumo especialmente

que es de la que hablamos hoy especialmente puede contribuir a la lucha contra la pobreza energética para los grupos sociales vulnerables

local y contribuye al desarrollo tecnológico

mundu osoan eguzkiari zerga edo impuesto al sol bezala ezagutzen da qué supuso brevemente este decreto pues el decreto le dio la puntilla

por las cargas y aranceles adicionales que suponía ahondó en una burocracia endiablada que hace en la práctica inviable el desarrollo del autoconsumo y supuso

al desarrollo de la modalidad de autoconsumo compartido es decir

y quieren compartir esas placas solares pues a día de hoy no lo pueden hacer bueno a día de hoy está en dudas porque ahora hablaremos

de todos modos y antes de este decreto el autoconsumo

y es importante señalarlo porque aunque hoy nos centremos por su gravedad en el impuesto al sol

es prácticamente imposible avanzar en el autoconsumo y yo creo que la mejor prueba de ello está en las islas porque en canarias por ejemplo en canarias no le afecta o de momento no le afecta una buena parte

y en canarias tampoco se están desarrollando las instalaciones de autoconsumo porque hay otro tipo de trabas

son dos uno es la burocracia asociada a todos los decretos es decir a toda la normativa y la segunda es la prohibición absoluta que había acerca del autoconsumo compartido aunque en la práctica lo que nos están diciendo los instaladores es que hay

que es la resistencia que están poniendo las distribuidoras normalmente grandes distribuidoras guretzat gai hau aspalditik izan da garrantzitsua

más que importante que haya habido una lluvia de demandas ante los tribunales de comercio que están empezando a suponer una sangría me remito a las sentencias de ciadi y que el autoconsumo eléctrico tan necesario para involucrar a la ciudadanía

los únicos reveses que han sufrido la política energética del gobierno el gobierno de cataluña llevó el decreto

al tribunal constitucional y este se pronunció el año pasado diciendo que anulaba los artículos diecinueve veinte veintiuno y veintidós con lo que queda anulado lo referido al registro a las instalaciones de autoconsumo y además anula el artículo cuatro punto tres

porque dice decía que en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores es decir cortaba

la posibilidad de autoconsumir en la modalidad conocida como autoconsumo compartido

no se pone a valorar el contenido concreto nos viene a decir que con este tipo de artículos se pisan las competencias autonómicas no existe

las competencias que tenemos para desarrollar la legislación básica del estado y en la explicación de la sentencia sale un poco lo que subyace de todo esto y sale la directiva

como un medio para garantizar que los edificios cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética y aquí también se define que para el año dos mil veinte y de cara a tener los edificios con menos consumos que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida

procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno es decir está hablando del autoconsumo así que ahora donde se leía los estados miembros adoptarán debemos incluir los estados miembros y las comunidades autónomas

en este caso la nuestra entonces la propuesta de hoy en su primer punto intenta precisamente incidir en el vacío

entendemos que puede ser un paso importante creemos que el desarrollo normativo que puede derivar de esta proposición puede tener encaje

ya que podrá habilitar no solo a particulares sino también a las administraciones

cuando llegue la propuesta del gobierno que tiene de plazo hasta fin de año pues volveremos a hablar sobre esto

que han aportado el pnv y el partido socialista y bueno casi mejor que lo expliquen ellos esta parte yo no sé con la que estamos de acuerdo evidentemente pero bueno digo por dejar

si se va a sumar a todo esto yo le invito a que busquemos la unanimidad en el primer punto nos parece importante

en lo que a nosotros nos parece mantener el error que sigue manteniendo madrid

un favor a madrid apoyando incluso el segundo punto sumarse al clamor que existe alrededor de esta ley

para que cuanto antes se haga el cambio o se anule pues mejor desde europa está a punto de entrar en las conversaciones finales el nuevo paquete de energía y clima y yo creo que desde ahí les van a tumbar el impuesto al sol sí o sí eso va a quedar claro bueno en definitiva

del paso que se va a dar hoy eso sí seguiremos vigilantes

acerca del tema más sin desarrollar eta hemen

osoz hago mía la reivindicaciones de

de este pleno porque están de huelga y no solo nos solidarizamos con ellas sino que como decía reivindicamos absolutamente

entendemos que es histórica no solo para las mujeres sino para la sociedad de este país

gai bat da instituzioetan dagoen gai bat da es cierto que antes era una cuestión que en las instituciones podía sonar incluso hasta

pero que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un tema no solo de rabiosa actualidad sino de un calado político

importante y se está convirtiendo entre otras cosas porque existe una preocupación social una preocupación social importante también política también institucional por tanto por la energía por sus costes

consecuencias que tiene para el medio ambiente por tanto estamos hablando de una cuestión que es tremendamente relevante en nuestros días pero sobre todo tremendamente relevante para el futuro

entendemos que las decisiones que ha tomado el gobierno de españa en los últimos tiempos no ayudan

creemos que hay instituciones que están avanzando en la buena dirección que incluso la sociedad puede estar avanzando en la buena dirección que incluso hay voluntad social voluntad institucional de avanzar en esta cuestión

no dejan de ser palos en las ruedas para avanzar en este tema y no es un tema que tampoco se nos haya puesto

de la pasada legislatura en esta misma cámara hemos tenido la oportunidad de debatir largo y tendido sobre esta cuestión y entendemos que es momento hay que avanzar tenemos la obligación de avanzar tenemos la obligación de alcanzar un sistema energético eficiente un sistema energético

eléctrico basado en energías renovables pero no de aquí

empezar a trabajar para que eso sea una realidad a corto plazo a medio plazo para que ese futuro sea un futuro en el que la reducción de

una realidad tangible para que sea compatible con los compromisos de la cumbre de parís para que se cumpla realmente y de manera real efectiva y tangible con esos compromisos por eso

la necesidad de un marco legal de un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico que sea una garantía y para que la generación

en la modalidad de balance neto sea también una realidad que eso sea posible que no tengamos trabas para que aquellas personas que quieran aplicarlo en su consumo doméstico puedan hacerlo sin ser penalizados para que nadie tenga que pagar impuestos adicionales por poderlo hacer por tanto entendemos que es un derecho

esa posibilidad creemos que estamos en un momento del debate político en torno al futuro de la energía en euskadi en un momento clave

determinante y vamos a comenzar el debate sobre un proyecto de ley y estamos habituados a hablar de la denominada transición energética no es algo

no es algo que nos pille de nuevas sino que además de haberlo debatido nos consta que se ha venido trabajando durante las últimas legislaturas en ello por tanto ahora

estamos comenzando a debatir políticamente en torno

que lo permita creemos que estamos en ese momento determinante en el que tenemos que ser valientes y avanzar en este sentido la enmienda transaccional a la que hemos llegado los grupos parlamentarios eh bildu nacionalistas vascos y socialistas vascos entendemos responde perfectamente a la preocupación compartida sobre este asunto no solo por los grupos parlamentarios representados en esta cámara sino incluso por la sociedad en general por las propias instituciones a las que me refería al inicio de mi intervención recoge la demanda

entre otros asuntos cuestiones que nos parecen fundamentales para que eso sea una realidad para que nadie tenga trabas a la hora ejercer lo que nosotros entendemos que es un derecho autoconsumo eléctrico por tanto por parte de nuestro grupo parlamentario solo

lo sucesivo seamos capaces de seguir avanzando en esta cuestión para lo que hoy

sea una solución una buena herramienta para poder autogestionarnos energéticamente eskerrik asko

perdonen la torpeza de este presidente eventual pero yo no elegí nacer hombre

ya ya e i a comenzar ta joder ya pero es

eskerrik asko prieto jauna efectivamente no es usted responsable de lo que

hace unos años lehendakari jauna sailburu legebiltzarkideok

es una de las opciones para la promoción de la generación distribuida de la que

mediante la cual en determinadas condiciones se consigue reducir las pérdidas en la red de distribución en la medida en la que se quieren alcanzar los objetivos asociados a las energías renovables

a día de hoy en estas políticas en europa la energía solar fotovoltaica es la tecnología de autogeneración más común y posee uno de los potenciales más importantes el balance neto es el intercambio de energía con la red es una forma de gestionar la electricidad de manera que la energía generada por el propio usuario

por energía consumida proveniente de la red es un intercambio diferido de unidades energéticas por ejemplo un kilovatio hora diurno por un kilovatio hora nocturno este tipo de balance neto

en términos económicos dado que el coste de la electricidad varía cada hora del día así podría darse un balance correspondiente a un intercambio de unidades económicas también

el ideal y en europa se va implantando poco a poco

además del balance neto existen otras políticas con las cuales desarrollar la energía distribuida como por ejemplo el autoconsumo

para el propio consumo en europa las propuestas de la comisión en los últimos paquetes de energía reconocen el derecho al autoconsumo y a la autogeneración los autoconsumidores son reconocidos a nivel de la unión europa y sus países tendrán que implementar un marco legalmente vinculante

almacenar y vender su propia energía en estas políticas europeas de promoción de la generación distribuida hay tres elementos importantes que se contemplan uno el derecho a vender energía autoproducida dos el derecho al autoconsumo compartido y tres la obligación por parte de los estados de simplificar los trámites por lo tanto para desarrollar este potencial de autoconsumidores hay que apostar por cambios en el mercado eléctrico y políticas que en muchos casos no están en marcha incluyendo el derecho a una retribución económica justa

en españa en este momento el balance neto no está regulado y se ha optado por el autoconsumo como política para la promoción de la generación distribuida a través del decreto novecientos barra dos mil quince que

aparte de otra serie de problemas no cumple en ningún caso con las directrices europeas que hemos mencionado en primer lugar

al eliminar en dos mil doce las primas a las renovables sustituyéndolas por un sistema de rentabilidad razonable estipulado por el gobierno

en segundo lugar en cuanto al autoconsumo compartido quedó directamente prohibido en dicho real decreto aunque como

cuando lo recurrió y declaró nulos varios de los artículos abriendo la puerta al autoconsumo compartido en edificios de viviendas urbanizaciones etcétera y en tercer lugar los trámites administrativos

porque queremos que se desarrolle un marco regulatorio favorable al autoconsumo o de lo contrario se transfiera la legislación básica en materia de regulación del sector eléctrico

forman parte de la legislación básica del estado no obstante vamos dando

es un claro ejemplo de ello y creemos que podemos seguir avanzando en la medida de lo posible queremos que el gobierno siga trabajando en la potenciación tanto de las redes eléctricas inteligentes

de promoción de la generación las energías renovables y la eficiencia energética para conseguir un modelo de energía eléctrica descentralizada y renovable apoyando todas las iniciativas que lo impulsan queremos que tras el fallo del tribunal constitucional del año pasado

un marco normativo propio para favorecer la implantación del autoconsumo eléctrico apostamos activamente

y el autoconsumo va a crecer y va a pasar a ser una realidad importante en la configuración del sistema eléctrico en el futuro cercano unas instalaciones de autoconsumo que hibriden soluciones de generación eléctrica renovable y almacenamiento eléctrico y la apuesta por la generación térmica renovable son

principales que tenemos por delante debemos seguir reclamando al estado un marco regulatorio favorable al autoconsumo de ahí el punto número dos de la enmienda transada a un autoconsumo responsable que cubra el consumo basal y con una regulación que de estabilidad legislativa y certidumbre a largo plazo es absolutamente

siempre hemos estado de acuerdo en la depuración de la tarifa eléctrica y que esta incluya únicamente los costes asociados al sistema eléctrico generación transporte y distribución el resto de conceptos que actualmente soporta la tarifa eléctrica habrían de ser sufragados por los presupuestos generales del estado es decir debemos pagar por la energía que consumimos y por el acceso y el mantenimiento de las redes en la medida

gozamos de uno de los que probablemente sea de los mejores sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica del mundo y ello conlleva unos costes de mantenimiento de las citadas redes que son sufragados lógicamente por los usuarios del sistema eléctrico

en cuanto a su contribución al mantenimiento de las redes implica necesariamente que otros sufraguen

normalmente incluyendo a aquellos consumidores más desfavorecidos que no pueden por razones económicas y de superficie acceder al autoconsumo y como no solo de modelo energético vive el hombre

cada ocho de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres a lo largo de la historia para participar en la sociedad en cualquiera de sus ámbitos en igualdad de condiciones y a esa conmemoración

desde y con mi perspectiva masculina también me sumo

que además de constituir un valor esencial para la democracia es además un factor clave y necesario para el desarrollo humano social

todos juntos debemos participar en la construcción de una sociedad inclusiva en la que todas y todos podamos desarrollar una vida plena digna y en igualdad de condiciones hablamos

no hay tarea mejor en la que utilizar nuestras energías para alcanzar una sociedad más justa eskerrik asko

tiene la palabra por el grupo popular la señora lópez de ocariz

efectivamente desde que se aprobará el real decreto de autoconsumo en españa más de dos años un real decreto que aparentemente no contentaba a nadie pero que facilitó que se empezará a desarrollar de forma progresiva este tipo de instalaciones en nuestro país y que ha convertido ha facilitado a los consumidores

y ya no solo consumen electricidad sino que también la producen y la pueden almacenar a la vez que gestionan activamente su consumo y por lo tanto podemos decir

real decreto que seguro que tiene fallos que un no real decreto y esto fue lo que nos dijeron

en la jornada de tecnalia que tuvo lugar en zamudio en el año dos mil dieciséis donde por cierto nos invitaros a los grupos políticos y estuvo

grupo nacionalistas vascos y grupo popular ni grupo socialista ni bildu acudieron

se ha hablado mucho en estos más de dos años y se ha exigido la aprobación de un esquema de balance neto en españa que permitiese al menos a nivel domestico

la totalidad de la energía solar generada en aquellas horas del día en que prácticamente no hay consumo en nuestras casas y hay quien dice hay expertos que

de autoconsumo de solares y expertos no de representantes del grupo popular ni del partido popular que existe balance neto en el articulado del real decreto de autoconsumo y hablan del artículo dieciséis punto dos y del anexo uno punto cuatro y tengo aquí un informe de una empresa que no los conozco yo expertos son y ahí está ahí lo dejo

que de sus ventajas principalmente hablan de las ventajas principalmente para autoconsumidores domésticos y que tal vez las empresas eléctricas

no están aplicándolo por desconocimiento o simple dejadez con el consecuente perjuicio económico que esto puede causar y yo creo que los gritos de algunos han contribuido a que las

en este caso porque sí que hay esa posibilidad en el real decreto y le he dicho los artículos

efectivamente puede ser más amplio pero este sí que vale para un periodo de horas y para un tipo de consumo muy doméstico el estado español se encuentra a la cabeza a nivel mundial a la hora de obstaculizar el autoconsumo eléctrico dice el señor otero en su iniciativa y decir que la actual normativa española en materia de

creemos si es así está avalado nosotros entendemos que está perfectamente alineada con las indicaciones recogidas en las propuestas

por lo tanto entendemos que no se ponen ninguna barrera o se desincentive el autoconsumo en españa

se han negociado el llamado paquete de invierno entre los ministros de energía de la unión europea en bruselas el consejo europeo avala el impuesto al sol del autoconsumo en españa

deben pagar el discutido peaje de respaldo pero es que el europarlamento aunque el ponente sí que lo introdujo inicialmente un español

esta causa y desde luego ni el europarlamento en sus conclusiones ni el consejo europeo han hecho ninguna referencia

se reunirán con el país presidente de la comisión

pero en ninguno de los dos se habla de eso que llaman ustedes impuesto al sol por lo tanto decir que lo que llaman ustedes despectivamente impuesto al sol se trata de una tasa

que señalaba que aquellos usuarios que tengan un sistema de generación autónomo como las placas solares en los tejados y estén conectados a la red eléctrica común

como costes del mantenimiento del sistema igual que el resto de consumidores los pequeños consumidores inferior a diez kilovatios no pagan dichos costes al sistema los autoconsumidores

los autoconsumidores deberán aportar proporcionalmente a los costes del sistema en sintonía con la normativa española tal y como lo ratifica el tribunal supremo

que fue desestimado por dicho tribunal esto lo ha dicho el tribunal supremo que ha desestimado

de las empresas de fotovoltaicas por lo tanto los tribunales están dando la razón al gobierno y el consejo europeo y el europarlamento también le ha dado la razón al gobierno no sé cómo acabará el

hoy no podemos decir que esté cuestionado esto en bruselas decir que el autoconsumo aislado cuando quien lo realiza no está conectado a la red no cuenta con este peaje

sustituye generación centralizada por distribuida reduciendo el consumo de la red pero el sistema eléctrico en su conjunto permanece y los costes fijos se mantienen eso supone que si no se cubren dichos costes fijos

es decir si usted hace autoconsumo yo hago autoconsumo y no pago

hace autoconsumo eso no es justo además el recibo hay que desengrasarlo está cargado de impuestos

de eso tienen ustedes bastante responsabilidad todavía estamos pagando la juerga del año dos mil diez aquella juerga que se montaron ustedes pues todavía la estamos pagando

la normativa actual de autoconsumo permite el desarrollo ordenado del autoconsumo y el reparto adecuado de las cargas del sistema lo que se ha pretendido

de las redes el tribunal constitucional ha anulado algunos artículos del real decreto y señor grajales ustedes que son tan escrupulosos con la normativa de madrid tan exquisitos en aquello que

si tan fantástico es hacer esas competencias por qué no lo recurrieron

de producción y los artículos que regulaban el registro centralizado de instalaciones ambos ámbitos deben ser regulados por las comunidades autónomas pero es que ustedes tenían que hacer la inspección de esas empresas y comunicar los datos a madrid y no lo hacían ahora muy bien ya lo tienen

fantástico para que hagan los deberes que no estaban haciendo y pasar los datos a madrid para que haya un registro único general

ahora ya lo tienen se lo ha dicho el tribunal constitucional que lo tienen que hacer

elimina la prohibición de compartir una misma instalación de producir pero les dice a las comunidades autónomas que deben regular el autoconsumo compartido de manera que

a abstener porque no han añadido algo que ha dicho el tribunal constitucional

y técnico del sistema eso es muy importante y a ver cómo lo hacen muy importante yo

al equilibrio financiero y técnico del sistema y el registro efectivamente hasta ahora existía un registro central gestionado por el ministerio de energía en el que todas las instalaciones de

pero las comunidades autónomas tenían que hacer las inspecciones para asegurarse de ello y no lo hacían y ahora me parece fantástico a ustedes eso no les hace ninguna gracia porque no lo estaban ejerciendo

por lo tanto señorías el registro

por las comunidades autónomas que comunicarán todos los datos al ministerio y habrá un registro por cada comunidad autónoma y un registro general y eso nos parece fantástico y bueno voy a esperar a la réplica pero es que aquí ustedes

aquí no hay debate de energía ustedes rehúyen cualquier debate de energía de transición energética y
así nos va así nos va gracias señora lópez de ocariz

es cierto que no elegimos ser hombres pero sí elegimos cómo comportarnos y también lo que décimos y lo que no décimos

no solo al autoconsumo eléctrico compartido que se va a votar hoy sino a todo el autoconsumo eléctrico y por lo tanto consideramos que este acuerdo que se vota hoy es insuficiente pero aunque es insuficiente actuaremos con la responsabilidad necesaria para votar a favor

y vamos a contraponer nuestra responsabilidad en el voto con la falta de responsabilidad que ha demostrado el gobierno vasco en esta materia cuando en dos mil quince el gobierno de españa promulgó el real decreto novecientos ya se sabía que era un real decreto totalmente nefasto para el sector un decreto que impide producir tu propia energía y consumirla cuando la necesites inaudito un decreto que te impide

inaudito las trabas que impone este real decreto las trabas administrativas insalvables el impuesto al sol llamado peaje de respaldo tiene un único objetivo garantizar y salvaguardar los beneficios de las grandes empresas eléctricas y

y castigar la producción de energía renovable porque la energía renovable ya es más barata que las energías fósiles y porque la energía renovable distribuida está poniendo

y este era el único objetivo de este real decreto mantener el negocio mantener el oligopolio poner puertas al campo en definitiva

el gobierno vasco durante varios años ha actuado como he dicho con falta de responsabilidad no ha hecho nada ya lo ha dicho la señora lópez de ocariz podían haber recurrido al tribunal constitucional como hizo cataluña no lo hicieron podían

ni una sola han puesto en marcha el gobierno ha sido cómplice mudo de esta ilegalidad cómplice mudo de esta ilegalidad por qué para no

y esta dejación de funciones este servilismo del gobierno

la primera es que la semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de una transición energética y hablamos de que en esta transición energética es imprescindible la energía renovable pues bien hoy podemos añadir

sino que esta energía renovable en euskadi el desarrollo de la energía renovable es imposible

con instalaciones pequeñas y sin el autoconsumo eléctrico no es posible en euskadi a día de hoy seguimos anclados en un siete por ciento de energías renovables desde hace diez años sin movernos ni una sola décima porque sin autoconsumo en euskadi las renovables

son imposibles mientras tanto en el dos mil diecisiete alemania ha producido ha instalado trece veces más

y claro esto tiene unas consecuencias evidentes y es que los costes energéticos para las empresas vascas han subido

por qué están subiendo los costes energéticos en españa y no están subiendo en alemania

cada vez es menos competitiva respecto a la alemana porque tenemos unos costes energéticos más altos porque no hacemos no producimos la energía de forma distribuida

es ir a donde el gobierno a pedirle que rebajen las tarifas a ciertos tramos eléctricos no han ido a pedirle que derogue este real decreto no lo ha hecho nuestro gobierno vasco ha aplicado las soluciones que no son incomodas para iberdrola y así nos va

a la ciudadanía y las empresas que quieren hacer autoconsumo eléctrico eusko jaurlaritzak

jaurlaritzaren jarrera horri daremos como digo nuestro apoyo

transacción entre el gobierno y eh bildu pero no se debe interpretar como un apoyo al gobierno sino como un apoyo al autoconsumo no va a ser un apoyo para seguir igual sino que va a ser un apoyo para impulsar los cambios que permitan desarrollar las energías renovables en euskadi no es un apoyo para mantener el impuesto al sol sino para construir un sistema eléctrico más justo y más equitativo y no es un

en manos de la ciudadanía vasca por lo tanto votaremos a favor porque buscamos el fin de los oligopolios y votaremos a favor porque creemos de verdad en la democracia
gracias gracias señor becerra van hacer uso del turno de réplica por eh bildu tiene la palabra el señor otero

quiero decir algunas cosas ahora que creo que me da tiempo señora lópez de ocariz

una es que cuando se dice que el autoconsumidor tiene que hacer frente a los costes del sistema yo no entiendo bien a qué se refiere usted porque el autoconsumidor siempre que esté contratando energía de sistema

y lo que no está teniendo en cuenta usted lo que no ha dicho es que esa parte de impuestos que no se recogen por parte del sistema de aquella parte

es bastante menor que el efecto que provoca en la bajada de precios a todos el hecho de que esa energía se esté produciendo la que se está autoconsumiendo porque todos sabemos

porque introduce energía en el sistema o la consume a precio cero el kilovatio entonces si hacemos balance con las dos el sistema sale ganando económicamente

es una medida completamente disuasoria para el uso del autoconsumo

usted dice se queja de que nosotros décimos que españa está a la cabeza

no lo décimos nosotros lo dice la agencia internacional de la energía que hizo un informe acerca de esto que decía que la normativa de autoconsumo de españa es la más restrictiva del mundo usted dice que

facilitó la implantación del autoconsumo yo le digo que hizo todo lo contrario

terminó de rematar la posibilidad de desarrollo de autoconsumo en españa y si no como ha dicho

a partir de ese momento españa tiene menos instalación de autoconsumo con cuarenta y pico millónes

que la región de bruselas menos de la cuarta parte de portugal

que el real decreto lo que hace es facilitar porque a partir del real decreto lo que ha habido es un bloqueo completamente absoluto

y los números están ahí usted si quiere niegue los números y niegue la realidad pero están ahí

se entiende bien con un ejemplo que suena a chiste pero

si usted se quiere instalar una placa una placa una sola placa que le cuesta doscientos euros más la instalación unos cuatrocientos euros en su casa y la quiere enchufar a la red este sistema actual lo que le va a pedir es

le va a pedir un punto de conexión la compañía distribuidora y eso le va a requerir

documentación de representación ficha catastral plano con propuesta del punto de conexión

tiene que solicitar un contrato técnico de la distribuidora que incluye un formulario de características principales de la instalación

condiciones técnicas del punto de conexión aceptación del punto de conexión certificado de cumplimiento y reglamento de puntos de medida certificado de gestor de red tiene que hacer la inscripción autonómica también

presentar justificante de cumplimiento del procedimiento administrativo justificante de acta de puesta en marcha declaración de las características técnicas de la instalación memoria técnica esquema unifilar planos de instalación certificado de instalación autorizado

certificado de cumplimiento y reglamento de puntos de medida certificado de gestor de red contrato técnico

la gestión de un contrato comercial para una placa solar que nunca

en portugal sabe usted lo que tiene que hacer para hacer esta misma operación

inscripción en un registro telemático en cinco minutos desde casa y usted me viene a decir

esto está pensado todo para que no haya ese desarrollo

reducir a la mitad los próximos dos años los peajes que soportan los consumidores energéticos que están sujetas a tarifas de acceso igual o superior a los treinta kilovatios es decir empresas y principalmente industria

tiene la palabra por el grupo socialistas vascos el señor

eskerrik asko mahaiburu jauna labur laburrean el señor becerra decía que el gobierno vasco no ha pedido que se

pero sin duda alguna los grupos parlamentarios que han firmado esa transacción

allí y donde haga falta por tanto vístalo como quiera pero no deja de ser una solicitud de derogación

llámelo como quiera no deja de ser una penalización no deja de ser un paso atrás no deja de ser un castigo lo puede vestir como quiera

una manera de impedir que aquellas personas que puedan optar al autoconsumo lo puedan hacer

mucho más factibles sin tener que sufrir una penalización me da igual en forma de tasa en forma de impuesto

como quiera la verdad es que sería un avance importante que no se penalizara y que precisamente

que fuera la incentivación dentro de esa necesidad que tenemos de iniciar de manera real y efectiva

energética más que deseable entendemos que ese sería un factor determinante para que socialmente

ese mensaje tuviera permeabilidad y la gente se lo creyera lo viera como algo factible como algo favorable

por esa opción que no deja de ser una opción de futuro por tanto entendemos que el camino no está por la penalización sino precisamente por lo contrario por la incentivación entendemos que en ese sentido el gobierno de españa tiene mucho que decir y mucho que hacer

por qué qué ocurre cuando lo que se genera no es suficiente para cubrir el consumo lo decía el señor otero hay gente que puede encontrarse en la tesitura de aun contando

el autoconsumo no tenga suficiente y tiene una doble penalización esa persona está siendo

general su autoconsumo no tiene ningún sentido entendemos que hay vías que hay herramientas que hay posibilidades para que esa penalización no se produzca

ha venido aquí a hacer poco menos que de boletín oficial estoy convencido que el señor arriola habrá tomado buena cuenta de todo lo que le ha dicho agradecerá su información como se lo agradezco yo pero en fin permítame que

que ver para creer ver para creer todo lo que nos ha contado

no solo fueran buenos deseos sino que realmente fuera efectivo y que el gobierno de españa

y en europa pues bueno estarán produciéndose los debates que se estén produciendo pero yo estoy convencido

son datos que bien que nos los podemos creer pero que no tienen sustento y sobre todo no tienen una visión

nos ponga en la tesitura de hacer posible esa transición energética que ya nos está demandando la sociedad y decía que no hay debate yo creo que ha habido debate más que suficiente no en esta legislatura es un debate que viene de legislaturas anteriores y que

protagonizado aquí y ha tenido oportunidad de debatir que los debates pueden ser de un mayor calado de un menor calado no le voy a discutir habrá habido debates que se hayan quedado en lo superficial y que no hayan sido suficientes bueno tampoco creo que en este parlamento y

en función de las competencias que tengamos podamos debatir en mayor profundidad creo que llegará ese momento y ese momento va a llegar a la mayor brevedad

en otras cámaras porque ya está en las instituciones porque ya está en la propia sociedad

afortunadamente nos adelanta en algunas cosas y nos aprieta y nos hará posible que esos debates a los que usted se refiere debates de mayor calado los tengamos

en esta misma cámara y para finalizar coincido plenamente con el señor otero aquel real decreto del dos mil quince acotó puso límites

fue poco menos que un veto a ciertas cuestiones y la realidad es que de alguna manera estamos a la cola de los países en los que supuestamente

sino en tantas cuestiones por tanto entendemos que una rectificación a tiempo sería un acierto y de alguna manera antes de que se pronunciara cualquier otro tipo de institución requeriría de un debate mucho más en profundidad mucho más sincero mucho más

gracias señor andueza por el grupo nacionalistas vascos tiene la palabra

bai eskerrik asko prieto jauna muy brevemente ya que creo que en fin

apoyar una enmienda transaccional que ni siquiera enmendó cuando se presentó hace un año tranquilo ni le van a nombrar consejero hoy por apoyar una enmienda que firma el partido nacionalista vasco que defiende o que anima al gobierno a hacer algo

estese tranquilo que no pasa nada usted hoy apoya ya sabemos el texto que apoya estamos todos de acuerdo pero no sé a qué viene aquí venir

que el gobierno en esta cuestión concreta no haya interpuesto un recurso es la única vía este grupo parlamentario

en esta cámara sí verdad es decir el grupo de podemos en el parlamento en las cortes generales ha intentado derogar ese mismo con eso tengo yo que decir

a mí lo que me parece tremendo es que cuando estamos hablando de una negociación que luego hablaremos del bucle pensemos que aquí hay quien tiene capacidad

sinceramente sin ningún complejo el haber intentado y avanzo seguiremos intentando que las empresas vascas competitivas respecto a las demás

y lo vamos a seguir intentando entre otras cosas porque de eso dependen muchos trabajadores de este país muchos trabajadores y muchas trabajadoras de este país yo estoy de acuerdo señor otero estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha planteado y en otras no

y estoy de acuerdo en que es una vergüenza que haya un estatuto de autonomía que después de cuarenta y tantos años siga sin cumplirse también creo que

que tiene el gobierno de turno en madrid y la estabilidad que le podemos dar los grupos minoritarios en determinadas ocasiones

creo que hayan sido capaces en decirnos cuál es la forma correcta

de ir avanzando en ese sentido pero en cualquier caso insisto que el gobierno vasco

no quiere decir en ningún caso que no nos hayamos manifestado reiteradamente en contra

en la que nosotros no podíamos entrar ahora parece que de manos

de la sentencia del año pasado sí vamos a poder hacerlo por eso el gobierno se compromete o nosotros le pedimos mejor dicho que se comprometa a traer un borrador

antes de final de año lo que es divertido es escuchar aquí

el autoconsumo en el estado español cuando realmente no solo no ha facilitado el autoconsumo sino que se ha cargado de raíz

es decir un negocio que iba que iba que iba a españa al país del sol y resulta que se está quedando a la cola frente a países como alemania por poner un ejemplo pues bueno

oiga tiene su tema aquello y lo mejor de todo es cuando dicen no oiga

haberlo haberlo quitado parece que el responsable de esto no es de quien hace es de quien no se queja o sea el que lo hace nunca tiene la culpa siempre es de los demás y termino señora presidenta voy terminando

dice la señora lópez de ocariz por terminar que revivimos todos los debates en tema de energía

señora lópez de ocariz no será por los que trae usted en cualquier caso yo le invito a que lo haga y seguiremos debatiendo aunque como le decía el señor andueza ahora mismo debatir con usted en estos asuntos es como debatir directamente

lo cual tiene poco digamos de aportación a la realidad y al futuro de lo que tiene que ser la transición energética en este país entre otras cosas

que lo que tenemos hacer es esperar a lo que nos digan otros que tenemos que hacer

enmienda que decía que el gobierno siga trabajando en la promoción de cogeneración que siga trabajando en energías renovables que siga trabajando en eficiencia

porque no hemos hecho nada en la promoción de la cogeneración nada en eficiencia energética estamos legislando una chapuza

no hemos hecho nada y me dice de energías renovables y modelos antiguos aquellas placas que por la noche también emitían energía

de qué modelo de qué modelo me está hablando y dice que yo me fijo en el boletín

empresa superpotente me fijo en las normas que rigen en esta cámara por lo tanto en eso tiene mucha razón señor andueza me hablaba de un modelo de promoción de modelo energético

debatido sobre algunos aspectos que afectan a la energía pero si algo y si lee las intervenciones que ha habido tanto en el dos mil quince como en el dos mil dieciséis no hemos debatido sobre un modelo energético no y porque este gobierno no ha querido

no se han puesto las bases de un modelo energético encima de la mesa hubo un inicio de pacto de eólicas de modelo eólico y se quedó paralizado y eso debió ser pues hace como ocho o diez años no por qué porque genera ruido y no queremos ruido como no queremos ruido tenemos frenado la promoción de las energías renovables

afín o la que mejor resultados tiene es la eólica y dónde las ponemos es que tenemos un problema y como no queremos ruido pues no avanzamos y ahí estamos

mire sabe cuál es la potencia renovable de la comunidad autónoma vasca a nivel lo que aportan sobre todo el total nacional el cero coma nueve por ciento ocupamos el puesto número

los números son malos no lo siguiente pero

a mí los porcentajes que tiene comprometidos el estado los estados miembros

aportar no no les importa no queremos un debate de modelo energético en esta cámara

pues háganlo a ver si de una vez tenemos ese debate y yo para terminar quiero decir que aquí alguien se ha referido a que hay compañeras de esta cámara que están de huelga

hay huelga para nosotras están de fiesta de día libre no sé no han venido pero no están de huelga

llegan ustedes y la vacían de contenido le quitan el balance neto

ya no se habla para nada del peaje de respaldo del impuesto al sol y se limitan a hablar de autoconsumo compartido pero aun así la vamos a votar

la actitud del gobierno sino nuestra apuesta por el autoconsumo fíjese lo malo que es este real decreto novecientos que en un momento con el tribunal constitucional que tiene ahora mismo españa

que ese tribunal constitucional le dé la razón a cataluña fíjese cómo tiene que ser el real decreto un real decreto que para solamente poner un panel solar si se incumple la normativa administrativa te puede poner hasta sesenta millónes de euros de multa

en los domicilios donde se hayan puesto paneles solares háganse una idea

parcialmente el tribunal constitucional pero más allá de eso

señor grajales hablar cuando habla de peaje de respaldo de privilegios y exenciones en ningún momento en españa

el impuesto al sol de españa es un treinta por ciento más caro que alemania y además es arbitraria

en dos mil doce en un informe que presentó

que refleje estrictamente la correspondencia entre costes y conceptos tarifarios habrá que implementar una tarifa de respaldo tal cual lo decía tal cual sin tener en cuenta la correspondencia

y zas en dos mil quince con el mismo nombre nos establecen una tarifa de respaldo

muchos decretos nos vienen ya escritos desde unesa que es la patronal de las grandes eléctricas pues este es uno de ellos

yo lo único que ha dicho es qué ha hecho este gobierno para derogar ese decreto nada vuelvo a decirlo nada en dos mil trece

ni lo recurrieron ni buscaron alternativas en dos mil trece este parlamento aprobó una proposición no de ley firmada por ustedes donde decía en caso de que entre en vigor el real decreto el gobierno vasco analizara propuestas concretas para favorecer el autoconsumo de energía eléctrica dónde están señor grajales no están en dos mil quince se aprobó otro esta vez no con su firma sí con la de los socialistas

en relación al despliegue del autoconsumo en la comunidad autónoma vasca dónde está ese informe señor grajales

por lo tanto yo no he mentido cuando he dicho que el gobierno no ha hecho nada en esta materia porque es que no ha hecho nada en esta materia pero le voy a dar dos datos simplemente para terminar para ilustrar hasta qué punto este peaje de respaldo que defiende este real decreto está lastrando la economía vasca

en alemania las instalaciones exentas son las de menos de diez kilovatios es decir las pequeñas sabe cuáles son las instalaciones exentas en españa

productores al revés aquí se beneficia al grande

en alemania el cuarenta por ciento de las instalaciones renovables están en manos de personas individuales el diez por ciento en manos de granjeros y granjeras

el siete por ciento en manos de los municipios y las regiones el once por ciento en manos de los bancos y el quince por ciento en manos de las ingenierías

solo está el seis por ciento de la energía renovable en alemania aquí toda esa es la consecuencia de que nuestras empresas ahora mismo tengan unos costes energéticos un sesenta por ciento superior a los que tenía hace diez años

en desventaja respecto al sector industrial alemán al francés y a otros muchos

lo que quieren es tener energía electricidad limpia y competitiva y hasta ahora el gobierno no ha hecho nada en esa materia y yo lo único que espero es que con el voto

bai si por puntos por favor sí un momento por favor no hay problema por votar por puntos